de apoyo público más allá de los planes estratégicos más allá del programa legislativo más allá del proyecto de ley de presupuestos aprobado

económico presupuestarias para el año que viene hemos aprobado como digo programas específicos de apoyo público valorados en quinientos cuarenta millónes de euros

empleo reactivación y sostenibilidad con estos programas de ayuda empresas con inversiones generadoras de empleo en margen izquierda y oarsoaldea formación de personas desempleadas empleo joven

ayudas a la internacionalización y la innovación desarrollo agrario desarrollo turístico o proyectos de actuación en suelos contaminados cambio climático y biodiversidad en el eje de desarrollo humano cultural e integración social hemos aprobado programas de acción humanitaria y atención a emergencias

actividades del tercer sector ayudas a las familias y conciliación dotación del fondo de servicios sociales producción cultural en artes plásticas

o promoción del uso del euskera en relación a las infraestructuras del país inversiones en el hospital universitario de araba

cuarenta millónes más en el plan de infraestructuras educativas centro de investigación

aprobación del canon de capitalidad para actuar en veinte proyectos en vitoria gasteiz son ejemplos de programas específicos de apoyo

por seguir con los ámbitos y los ejes de actuación en el ámbito de convivencia y derechos humanos yo destacaría el diez de marzo celebramos el día europeo de las víctimas del terrorismo

ambos con la participación de todos los grupos parlamentarios de las instituciones y de buena parte de representantes de la sociedad vasca son ejemplos de avance en la normalización de la convivencia hemos abierto una nueva convocatoria de ayudas en el ámbito de cooperación al desarrollo incrementando las dotaciones presupuestarias

conoce usted la situación del grupo empresarial cel

un grupo empresarial que está pasando en estos momentos por una situación

que pertenece a nuestro sector papelero en el que trabajan más de trescientos trabajadores y trabajadoras y en el que tiene

su gobierno alguna responsabilidad en el devenir de la situación de estas trabajadoras y trabajadores el gobierno

a través de la empresa de gestión de capital riesgo controlaba de manera indirecta el cuarenta por ciento de las acciones de este grupo

el pasado veintiséis de mayo al parecer la dirección de la empresa comunica a los representantes de las y los trabajadores que habían presentado en el juzgado un preconcurso de acreedores y además les solicitaban nada más y nada menos que una reducción salarial del veinte por ciento posteriormente

a varios centros de trabajo se les ha cortado la electricidad además hoy mismo nos contaban los trabajadores que de manera abrupta se les cortó la electricidad lo cual podía haber tenido consecuencias graves porque allí se trabaja con maquinaria

según la representación de los trabajadores de las decisiones de la dirección del grupo de dejar de pagar las facturas de la luz desde el mes enero

sin previo aviso se les había comunicado que los principales accionistas del grupo entre ellos como decía el gobierno vasco

del grupo a nuestro modo de ver hay una responsabilidad directa del gobierno vasco en la situación de esta empresa y del futuro de los empleos que es lo que sobretodo nos preocupa y sabemos que el gobierno vasco tiene herramientas suficientes y necesarias para garantizar

es rentable por eso nuestra pregunta es qué medidas concretas y urgentes piensa tomar el gobierno vasco
para salvaguardar los puestos de trabajo en este grupo empresarial eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

señor hernández y para conocimiento público y también de las personas trabajadoras del grupo cel

conviene aclarar que mantener la actividad y salvar los puestos de trabajo ha sido un empeño permanente del gobierno vasco desde el año dos mil once cuando la empresa kimberly clark se encontraba avocada al cierre

buscó soluciones para la continuidad de la empresa a través de la entrada de inversores locales

el objetivo se logra y se crea la nueva empresa cel

corresponden al fondo público de capital no a la empresa sino al fondo

de forma complementaria este fondo aporta un prestamo participativo de dos y medio millónes de euros

es temporal y coyuntural desde el primer momento no estructural se establece su salida desde el primer momento para dos mil catorce

situación que así ha sucedido este mismo año por parte de quien ostentaba un cuarenta y cinco por ciento

entre el año dos mil once y el año dos mil diecisiete la empresa evoluciona con muchas dificultades

y con noventa trabajadores se incorpora a cel las cuentas de cel en el periodo dos mil doce dos mil dieciséis son negativas

hoy no existe participación pública en el capital de la empresa ahora bien sí se mantiene vivo un prestamo de dos millónes de euros

ha sido novado en varias ocasiones para contribuir a mantener la actividad y el empleo de la empresa como ejemplo del compromiso también del fondo público

bueno entiendo que a la pregunta de qué medidas concretas y urgentes van a

para salvaguardar los puestos de trabajo usted me está respondiendo que nada o que desde luego nada nuevo creo que la situación de este grupo en el que el gobierno vasco a través de esa sociedad había invertido es suficiente razón para que en un momento complicada donde están en peligro real

el gobierno se replanteé qué va a hacer o es que ustedes simplemente nos dicen lo que ha pasado cuál era la previsión de lo que iban a hacer abandonan aquello y entonces les da exactamente igual lo que pase con estos trescientos puestos de trabajo de un grupo empresarial en el que el gobierno vasco invirtió un dinero público mayor o menor

que este gobierno cuenta con herramientas suficientes y necesarias

sea viable y salvar los trescientos puestos de trabajo la empresa ha facturado positivamente con beneficios en el año dos mil catorce y en el dos mil dieciséis ha aumentado la facturación de cuarenta y cinco millónes a sesenta y cinco millónes

es viable si el gobierno vasco se compromete el gobierno vasco tiene herramientas para comprometerse y tiene responsabilidad en el devenir de la empresa de los últimos años porque ha sido parte de su dirección
por lo tanto a nosotros nos parece que el gobierno vasco no puede mirar para otro lado y tiene que implicarse en la solución de este conflicto eskerrik asko eskerrik asko

de los acontecimientos en el grupo cel mire todas las vías de apoyo a la actividad productiva y a la industria del gobierno vasco están a disposición de la empresa

ahora bien corresponde a los socios de cel la puesta en marcha de nuevas actuaciones la realización de inversiones y aportaciones económicas

de publificación de empresas no ya no se trata de eso señor hernández usted sabe que la normativa europea y la normativa estatal impiden ir más allá

en mi primera intervención y de esta forma la empresa puede adoptar las medidas necesarias para mantener la actividad y el empleo

plena el gobierno no puede garantizar la viabilidad de cada empresa en un mercado abierto ahora bien

son numerosos los ejemplos en los que socios y trabajadores han sacado la empresa adelante y en este empeño el gobierno siempre ha estado y estará a su lado

vamos a seguir trabajando en el impulso de planes de desarrollo comarcal con el objetivo de dinamizar la actividad económica y generar oportunidades de empleo así lo estamos insistiendo también

siempre hemos sido conscientes de la situación que sufre en enkarterriak y así lo demuestran las actuaciones que hemos

gracias presidenta buenos días a todas y a todos señor consejero la actividad comercial tiene una indudable relevancia en términos de creación de riqueza y empleo y el sector comercial vasco se enfrenta

con el principal reto de acomodarse a los nuevos hábitos de compra de las personas consumidoras y el comercio en euskadi sigue avanzando en la globalización

y de afianzamiento y el comercio minorista vasco aporta valor añadido y además contribuye a dinamizar y a dar vida a los entornos urbanos

la historia de la actividad comercial la atención diferenciada el conocimiento del producto y el mantenimiento de una clientela fidelizada

sin embargo chocan en muchos casos con ir más allá de la demanda existente con reinventarse como empresa con la innovación etcétera algo que sin embargo resulta necesario para enfrentar cambios estructurales profundos

y en el acuerdo de gobierno los socialistas vascos nos hemos comprometido a apoyar el comercio local como un elemento fundamental para la consolidación del empleo y la dinamización de nuestros pueblos y de nuestras ciudades y los socialistas vascos siempre hemos estado

en impulsar de manera decisiva el modelo comercial vasco y pretendemos lograr un comercio que además de desarrollado sea eficiente sea competitivo

adaptados a las necesidades de las personas consumidoras un formato además equilibrado en su diversidad equilibrado en su distribución en la accesibilidad territorial

de nuestros pueblos y ciudades en euskadi consolidando además como un elemento importante profesionalizado y los socialistas vascos creemos necesario dar a conocer las herramientas que el departamento de turismo comercio y consumo que usted lidera pone a disposición de la consecución del objetivo de apoyar el comercio local del impulso

y de la dinamización económica de pueblos y ciudades así como para gestionar con eficiencia los espacios urbanos le preguntábamos señor consejero si tiene previsto

con su análisis sobre el sector comercial en euskadi le explico en qué momento estamos

y la competitividad del comercio en concreto refiriéndome al programa hirigune el objetivo de este programa es potenciar la cooperación empresarial priorizando una relación creciente

puesto que entendemos que el fortalecimiento de estructuras asociativas facilita la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías aumentando la productividad y la eficiencia

dos mil veinte dentro del eje un crecimiento sólido con más y mejor empleo y dentro del apartado de promoción de turismo comercio local y consumo responsable se encuentra el compromiso número treinta y uno que dice así fomento de la competitividad del sector comercial vasco entre las iniciativas de ese compromiso se recogen la de apoyar el comercio local e impulsar su competitividad como elemento fundamental para la consolidación

y ciudades gestionando asimismo de forma eficiente los espacios

es imprescindible el apoyo a mecanismos de colaboración público privada impulsando acciones de cooperación sectorial y zonal dentro del propio entorno municipal mejorando el posicionamiento de nuestras empresas

introducimos en el programa hirigune importantes modificaciones normativas que deben servir

destaca la inclusión de un nuevo tipo de beneficiario para las actuaciones a desarrollar por parte de los ayuntamientos concretamente

y una tasa de desempleo superior a la media de la comunidad autónoma estos ayuntamientos podrán solicitar ayudas para la elaboración de planes estratégicos

de una herramienta que sirva de soporte y ayuda al desarrollo de actuaciones que puedan generar actividad económica y por ende empleo en aquellos municipios con una entidad suficiente para la utilización como soporte de un estudio de las características de un plan estratégico

mínimos que deben recoger la elaboración de estudios y planes estratégicos actualizándolos a las necesidades actuales

a diversas empresas de la comunidad autónoma vasca y se amplían las ayudas incluyendo o modificando algunos de los activos que se consideraban financiables hasta el momento así

ya que los posibles beneficiarios nos trasladaron esa necesidad por otro lado se amplía la financiación en señalítica comercial incluyendo el turismo de compras

y la turística de los municipios hemos creído que una de las mejores opciones para optimizar los recursos públicos que empleamos ha sido el adecuar el programa para el fomento de actividades que atraigan a la población a espacios adecuados y atractivos para el desarrollo de la actividad comercial

de retenerla nuestras políticas deben estar dirigidas a la generación de riqueza y a la creación de empleo sostenible y de calidad todo ello en un escenario como el actual

y en el que la excelencia y la calidad en el producto y en el servicio son cada vez más determinantes en la elección de compra y por lo tanto en la consecución de resultados muchas gracias

gracias señora presidenta buenos días señor lehendakari consejeros señorías el lunes hizo usted visita a cataluña había motivo

al término de la misma emitieron un comunicado tuvieron una reunión larga eso se ha interpretado como un gesto de apoyo

naturalmente también la consecuencia es el proceso que lidera es verdad que el presidente puigdemont anda escaso de amigos en españa y también en europa en el resto del mundo

se le puede achacar a usted al día siguiente el señor erkoreka en

ya aclaró que no compartimos desde el país vasco y no comparte el gobierno la estrategia de la generalitat de cataluña y la estrategia de puigdemont una estrategia unilateral que está llevando

por tanto yo le pregunto y es razonable que usted pueda aclarar hoy aquí si está más de acuerdo consigo mismo el lunes o con el señor erkoreka el martes cuál es la posición si las dos son compatibles

lo aclare se lo planteo en buen término y no tengo intención

del atentado de hipercor y mantuve sí una reunión con

lo había mantenido por no citar otros ejemplos el fiscal general del estado

no creo que esta visita del fiscal fuera un error como también se ha interpretado que la mía ha sido un error mire

porque nos ha permitido un conocimiento más completo de la situación política e institucional en cataluña en euskadi en el estado y en europa

por compartir puntos de vista nosotros abogamos por la institucionalización del derecho de la ciudadanía a ser consultada de manera legal y pactada sobre su futuro

y digo que de aquella reunión también insisto en que la legalidad no es inmutable debe servir para resolver los problemas políticos y sociales porque si la

que ahoga las aspiraciones democráticas no sirve para solucionar los problemas de las naciones y de los pueblos

cambiarla y adaptarla compartimos la necesidad de un proceso dialogado para una reformulación del estado que responda a las diversas realidades nacionales

cada uno desde su realidad nacional y su situación política e institucional propia

una reunión para mantener el diálogo político nunca es un error el diálogo es la esencia de la política y compartimos en esa reunión la necesidad de preservar el diálogo y nosotros haremos lo que esté en nuestra mano para lograrlo desde el respeto mutuo la voluntad de diálogo implica

el objetivo de llegada eskerrik asko eskerrik asko

gracias señor lehendakari me tranquiliza usted algo no del todo pero yo le veo efectivamente una línea mucho más matizada

cuando realmente lee uno el comunicado se dicen cosas que suenan un tanto pintorescas

quiere hacer un referéndum de autodeterminación para declarar la independencia lo cual no parece que sea profundizar el autogobierno sino destruirlo

a la reflexión que hacen ustedes de que la ley es un corsé yo le quiero decir que la ley tiene como objetivo proteger

y que forman una nación de ciudadanos que eso es lo que estamos defendiendo desde el ámbito constitucional por tanto claro plantear que eso puede quebrarse es como le voy a poner un ejemplo a lo mejor le va a parecer a usted mucho más bajo

bizkaia se erige nación cosa que ya hemos escuchando en tiempos pretéritos y decide separarse de la comunidad autónoma hombre algo tendríamos que decir alaveses y guipuzcoanos

en los que en el estricto respeto de los derechos de los ciudadanos podemos enfrentar el diálogo el diálogo esta legislatura estos seis meses que usted ha engrosado como los más importantes de la vida de euskadi en términos

el diálogo está siendo muy fecundo el diálogo está trayendo tranquilidad hay una mayoría moderada en la que usted está apoyando la acción del gobierno en esta cámara

en el apoyo y el soporte de esa mayoría de moderación porque eso es lo que demanda la sociedad vasca que busque la estabilidad

que siga en la línea de colaboración con el gobierno

histórico y que entienda que nosotros que queremos seguir también en esa tarea de colaboración y de entendimiento no le vamos a poder seguir si usted se lanza a un camino de radicalidad de enfrentamiento de ruptura como el que siguen en cataluña no siga el camino de cataluña confío en que usted no quiere ir por ahí pero si se apoyan propuestas

se quedará colgado de las fuerzas radicales eso han hecho algunos en cataluña han destruido su partido han dividido a la sociedad

la responsabilidad de gobierno han llevado a una quiebra financiera su comunidad y por tanto lo único que han producido es enfrentamiento dolor y esterilidad

desde el principio también de lo que sea beneficioso para el conjunto de la sociedad y en el beneficio del conjunto de la sociedad le pregunto las leyes son inmutables no se puede cambiar las leyes cuando hay una mayoría de la sociedad que aspira a que las leyes cambien también

que podría y debería dar concretamente tres pasos primero

y reconocer la existencia de un conflicto entre voluntades sociales mayoritarias

se manifiestan de forma divergente en cataluña en euskadi y en el resto del estado español segundo el gobierno español y el partido popular deberían asumir su responsabilidad sí su responsabilidad

esta cuestión se inició con la recogida de firmas entre otras razones

y ahora deben reorientar su estrategia y trasladar el conflicto del marco de enfrentamiento agonístico

y tercero el gobierno español debería abordar el conflicto territorial aprovechar los foros de diálogo político para buscar soluciones para conciliar y confederar democráticamente las aspiraciones mayoritarias de las sociedades españolas catalana y vasca nos debemos a un principio de responsabilidad tenemos un reto estratégico evitar cualquier forma de fractura social o política

y acuerdos basados en la bilateralidad yo haré todo lo que esté en mí mano para favorecer este cambio estratégico en el estado porque con voluntad el acuerdo

hay despropósitos de gestión que se ven venir y que si no se afrontan y no se corrigen

como usted sabe desde el comienzo de la presente legislatura en el territorio foral

y una vez que comenzó la legislatura foral a andar la diputación foral de gipuzkoa puso en marcha una idea entendiendo que el ecosistema empresarial guipuzcoano

reclamaba que pudiera existir en el territorio histórico de gipuzkoa con vocación más amplia pero ubicado en gipuzkoa un centro de ciberseguridad un centro de ciberseguridad que respondiera a una amenaza real que se está produciendo ya en el mundo occidental y no occidental y que

ya cuentan con mecanismos suficientes no bastantes probablemente pero que cuentan con mecanismos de respuesta y que parecía razonable que la entidad pública en este caso la diputación foral

una necesidad de protección sobre esto venían trabajando a lo largo de dos años y hace pocos días

la diputada foral del ramo anuncia los detalles o avanza detalles de este centro de ciberseguridad coincidiendo el mismo día el gobierno vasco anuncia también

de similares circunstancias en álava hay quienes han planteado estos dos centros como una cuestión de choque

de lucha entre territorios de lo que estamos hablando y sobre lo que le queremos preguntar hoy es sobre el

cómo es posible que en un mismo territorio como el nuestro de una dimensión que todos ustedes conocen con una potencialidad determinada vaya a haber aparentemente a partir de otoño dos centros públicos dedicados exactamente a lo mismo y además cuando ni tan siquiera se han puesto de acuerdo o han hablado o han intentando convergen las dos instituciones

el de la diputación foral de gipuzkoa medio millón es decir señor lehendakari esto es un poco despropósito

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor sémper desde el respeto

yo tengo que decirle que el compromiso de crear un centro de ciberseguridad está recogido en nuestro programa de gobierno y además es que no es nuevo

la digitalización de las empresas la fabricación avanzada la interconexión entre las personas y las máquinas

novedoso y eso es lo que nosotros analizamos ya la legislatura pasada los ataques informáticos masivos tal y como hemos podido comprobar recientemente

es el objetivo del centro vasco de ciberseguridad una unidad específica dentro de spri este centro incorpora

coordinación de infraestructuras críticas de euskadi incluidas en el programa apiceus

que es responsable de la seguridad informática interna de la administración pública la consejera

a instituciones y empresas durante la fase de maduración del proyecto y también a la diputación foral de gipuzkoa siempre

fue la diputación foral de gipuzkoa la que manifestó su intención de poner en marcha su propio centro para dar respuesta específica a las necesidades de las empresas del territorio esta situación yo entiendo que no tiene por qué suponer duplicidad ni solapamiento

sino la coordinación y la colaboración porque nuestro objetivo por lo menos el del gobierno vasco es sumar

de la ubicación del centro no es tanto si araba o si gipuzkoa como usted ha dicho

araba no el centro de ciberseguridad del gobierno vasco es para euskadi esté donde esté y la decisión sobre la ubicación de los centros o del centro

de nuestra singularidad territorial que se sustenta sobre la identidad de tres territorios históricos con unas particularidades propias sea compatible con la gestión de un gobierno de ámbito general el que usted representa esto no debe de ser un problema salvo que los políticos hagan mal su trabajo y lo conviertan en un problema de duplicidades y esto es una duplicidad evidente señor lehendakari

un problema mire a la diputada foral de gipuzkoa le preguntaban sobre esta materia en un periódico y le preguntaba el periodista cómo puede anunciarse dos centros dedicados a la ciberseguridad en un país de poco más de dos millónes de habitantes ella respondía

y que cada cual saque sus conclusiones si va a haber dos centros es porque no se ha llegado a un entendimiento hasta ahora

oiga a lo mejor es más complicado todo de lo que parece pero yo le invito y le pido que llame al diputado foral de gipuzkoa

vamos a evitar más gasto vamos a evitar duplicidades vamos a hacer un buen centro para el conjunto de euskadi para nuestras empresas y para nuestras instituciones que respondan a una amenaza real

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor sémper y qué me dice usted a mi cuando estoy mirando por los tres territorios mire usted puede defender

porque el mundo de la ciberseguridad está naciendo y crece a una velocidad vertiginosa y no solamente desde los centros públicos

el gobierno vasco va a poner en marcha un centro con la vocación de servicio a todo euskadi a todos los territorios

tanto públicos como privados que existen o que vayan a poner en marcha en el futuro la clave del éxito es estar conectado en red con todos los demás mire nosotros manifestamos nuestra disposición abierta a trabajar de forma complementaria con gipuzkoa y los demás territorios para prestar un mejor servicio en materia de ciberseguridad esta es nuestra vocación y es nuestro deseo señor sémper

puertas abiertas a la colaboración institucional y también a la colaboración público privada en este ámbito y en todos los demás eskerrik asko

usted presentó el estudio actitudes de la ciudadanía hacia el medio ambiente

sociológicas en el cual se analizaba la percepción ciudadana acerca de diferentes cuestiones relacionadas con el medio ambiente entre los resultados de ese estudio figuraba que la primera preocupación

sobre la contaminación de los coches y otros vehículos de transporte

la contaminación de las fábricas y la contaminación del aire eso quiere decir que

cuatro de ellos tienen que ver con la contaminación del aire cuando se les preguntaba respecto a esa misma percepción en cuanto a los problemas a nivel de euskadi

se repetía el resultado cuatro de los principales problemas de los cinco principales problemas tenían que ver con la calidad del aire

exactamente lo mismo cuatro de los cinco primeros relacionados con la calidad del aire claro

la actitud yo diría complaciente del gobierno respecto a la calidad del aire que tenemos en euskadi ustedes su departamento

cuando existían los problemas graves de contaminación en madrid que en euskadi la calidad del aire cumplía con los límites exigidos claro desde el grupo elkarrekin podemos eso nos genera de alguna manera bueno nos produce curiosidad saber si

por eso les preguntamos en enero pasado acerca de cuál era la gestión que hacían de la red de calidad del aire que tiene euskadi por un lado les preguntábamos acerca de cómo cuantificaban y colocaban las estaciones de calidad del aire medición y después les preguntábamos qué hacían

el objeto de esta interpelación es en referencia a esta segunda cuestión es decir qué se hace con los resultados de la medición de la calidad del aire en euskadi

porque bueno cuando en la mayor parte de las comunicaciones del gobierno como he dicho en la pasada del mes de diciembre sacaban ustedes una nota de prensa diciendo que

los límites legales cumple con los límites legales y bueno yo entiendo que eso para la gente es una obviedad para eso está el gobierno para que se cumplan los límites legales

a la gente le preocupa cómo puede afectar la contaminación del aire a su salud la contaminación en general pero la contaminación del aire de forma específica porque en el mismo

la ciudadanía hacia el medio ambiente consideraba la gente que la contaminación del aire en una escala de uno a diez tenía una importancia de ocho coma nueve solo superado por la contaminación del agua es decir a la gente le preocupa la calidad

de manera que la respuesta a la pregunta que le he hecho es para qué queremos los datos

para ver si los límites de contaminación están afectando o no a nuestra salud

qué van a hacer las administraciones con los datos que recogen la red de calidad del aire cómo esos datos se van a utilizar para proteger su salud

como está sucediendo ahora mismo por ejemplo en madrid o en otras grandes ciudades donde las administraciones cuando tienen datos de que se superan ciertos valores

y aquí es donde vemos que la respuesta del gobierno y de las administraciones vascas empieza a flojear porque si miramos la normativa en materia de calidad del aire hay tres tipos de límites uno

es el que habitualmente suelen utilizar ustedes para hacer los informes y las notas de prensa diciendo que todo está correcto el valor límite es un valor

es un límite que no debe superarse una vez alcanzado pero que supone un riesgo a medio plazo si se supera puntualmente no pasa nada ese es el que habitualmente

existen otros dos límites uno es el llamado umbral de información ese es un nivel de contaminación a partir del cual una exposición de breve duración

problemas respiratorios asma insuficiencias etcétera

las administraciones competentes deben suministrar una información y lo dice así la normativa inmediata y apropiada y luego tenemos un tercer nivel

una exposición también de breve duración supone ya un riesgo para la salud humana para toda la población y este nivel exige la adopción de medidas inmediatas por parte de las administraciones ya no solo vale informar sino que hay que adoptar medidas inmediatas

que son como digo niveles de contaminación que suponen un riesgo a corto plazo son los que están motivando en otras ciudades como madrid o parís

son límites que se miden en un nivel de tiempo muy corto en niveles horarios y bueno lo que dice la normativa es que cuando se superen bien el umbral de información

de los niveles registrados o previstos y de las medidas que vayan a adoptar entonces a elkarrekin podemos nos preocupó saber hacen las administraciones porque claro es decir la adopción de medidas igual que el suministro de información

las tres capitales y barakaldo y la respuesta ha sido ciertamente preocupante

tienen ahora mismo un protocolo ni de información ni de actuación en el caso de que se superen ni el

les preguntamos también a ustedes qué hacían con los datos y ustedes

alguna respuesta de los ayuntamientos ha sido bueno ya están en la página web

están en la página web ustedes nos han dicho por escrito que esos datos además de colgarlos en la página web se le suministran a sos deiak en el caso de que se produjeran incidencias pero claro

no saben qué hacer algún ayuntamiento incluso ha dicho que el protocolo le corresponde hacerlo al gobierno vasco con lo cual incluso desconocen la ley

entonces por un lado nos está preocupando esta cuestión pero por otro lado nos preocupa otra que también es importante y es que

el no superar los límites legales que está bien por sí mismo con la meta que sí sería deseable de conseguir que los niveles de contaminación atmosférica sean lo suficientemente bajos

la propia organización mundial de la salud considera que la contaminación del aire por debajo de los límites legales también es perjudicial para la salud y existen múltiples

sobre trescientos mil personas en toda la unión europea donde se decía que la exposición incluso a niveles por debajo de los valores límites definidos por la unión europea

con la contaminación atmosférica tenemos un problema y es que no hay niveles seguros no hay niveles seguros y por lo tanto lanzar la información de que

de los niveles legales ya no hay problema es en cierto modo es erróneo

que sus directrices de calidad del aire son mucho más restrictivas que los límites legales por ejemplo que tiene españa o la unión europea

sobre la calidad del aire del estado en dos mil quince dice respecto a euskadi que la contaminación por partículas afecta principalmente a zonas industriales del alto y bajo nervión

alto deba goierri además de a las tres capitales y dice además este informe que se supera el valor medio diario o anual recomendado por la organización mundial de la salud es decir que frente a la información que proporciona el gobierno de que no superamos los límites legales que es cierto tenemos

por lo tanto nos parece importante que su departamento establezca una línea de trabajo con el departamento de sanidad

dirigida a analizar dónde y cuándo se están superando estos límites marcados por la organización mundial de la salud y hacer planes de mejora que permitan superar estas situaciones por lo tanto

de esta interpelación consideramos que la actuación del gobierno puede mejorar en dos sentidos uno en mejorar la coordinación de las actuaciones con todas las administraciones para poner en marcha planes de mejora y dos con el departamento de sanidad para ver cómo se cumplen los límites

sobre los criterios de diseño en principio de la calidad del aire en euskadi y se lo voy a contar como sabe usted la red actual es consecuencia de un proceso histórico la primera red automática se instaló

en el año setenta y cinco en el área del gran bilbao entonces se producía en este ámbito

y la red fue asumida por el gobierno vasco en mil novecientos ochenta y uno y fue ampliando al conjunto

que componen euskadi siguiendo los criterios establecidos por las distintas directivas europeas los actualmente vigentes son los fijados en el real decreto ciento dos barra dos mil once que traspuso la directiva doscientos ocho barra cincuenta de calidad del aire

la ubicación de los puntos de medición obedece a la mejor identificación de los contaminantes

y al medio ambiente para lo primero las normas indican que deben estar situadas en zonas de aglomeraciones que registran las concentraciones más altas a las que puedan ver y llegar a verse expuestas durante un periodo significativo de forma directa o indirecta esto es en núcleos urbanos más importantes o en las áreas

para la protección de los ecosistemas naturales y la vegetación los puntos de medición deben estar situados a una distancia superior a veinte kilómetros de las aglomeraciones

edificadas instalaciones industriales o carreteras con el fin de medir la contaminación de fondo

y además la normativa también establece el número mínimo de cabinas por contaminantes y población

y en este sentido euskadi supera de forma amplia el número mínimo fijado

distribuidas por todo el territorio cuarenta son del gobierno vasco trece de empresas privadas centrales térmicas petronor zabalgarbi etcétera

y es el departamento el que valida todos los datos de todas estas estaciones además de estas estaciones móviles

disponemos de seis unidades móviles para evaluar problemas concretos de emisiones y situaciones de emergencia y entre estas tenemos dos

emergentes como usted también sabe

teniendo en cuenta la orografía y los contaminantes en el caso

la siguiente zonificación encartaciones alto nervión

se divide euskadi en cinco zonas litoral bilbao barakaldo

en total por capitales tenemos en bilbao cuatro estaciones maría díaz de haro arraiz parque europa y en san sebastián cinco puyo ategorrieta añorga easo y avenida tolosa en vitoria cuatro

cada estación fija cada contaminante en continuo las veinticuatro horas del día

días del año y los resultados se trasladan automáticamente cada quince minutos

de una hora es decir cualquier ciudadano puede conocer

en la página web del departamento así como también los registros diarios y anuales una calidad que en términos generales es buena y no lo digo para

sino porque es así si no fuera así lógicamente también tendría que decirlo

lo cierto es que las concentraciones de dióxido de azufre han descendido de forma sensible en los últimos años

aunque es cierto que en el caso de dióxido de nitrógeno ligado al tráfico y especialmente a los vehículos diesel

en los principales núcleos urbanos pero sin llegar a superar

no se han producido episodios que hayan determinado la necesidad de establecer protocolos de alarma por la superación de niveles contaminantes

y para este sí se ha diseñado un sistema de alarma dentro de la red de forma que avisa a los técnicos del servicio cuando se está cerca de alcanzar

habida cuenta de esto en concreto sobre el ozono

que estamos entrando en la campaña estival que influye sobre los niveles de esta sustancia en esta legislatura se está trabajando en la elaboración de un protocolo de alertas y avisos

como se ha podido comprobar esta misma semana en la página web del departamento en los próximos días se pasará a publicar este protocolo que sí incluye como se ha dicho un sistema de avisos por sms tanto al propio departamento como a los técnicos de salud

y también a la población en general dicho protocolo además incorpora una serie de recomendaciones y consejos a la población

en conjunto de los factores climatológicos que permiten prever la situación posterior en el caso de detectarse

se actuaría de la misma forma aunque hasta el momento

esta necesidad en cuanto a las trece empresas que cuentan con sistemas de medición integrados en la red de calidad del aire

no obstante sus titulares están obligados por las autorizaciones ambientales a dotar sin demora y sin necesidad de requerimiento alguno y poner en conocimiento

las medidas de evitación de nuevos daños cuando se haya causado una contaminación atmosférica en la instalación del titular

esto es así además el servicio de inspección de la viceconsejería de medio ambiente también tiene recursos para actuaciones ante cualquier incidencia ambiental como una gestión de avisos que cubren las veinticuatro horas todos los días del año en lo que se refiere a humos partículas gases y olores la actuación se inicia con la recepción del aviso

se recaban todos los datos y en caso necesario se establece la coordinación a través

realiza una gestión integrada de todos y una acción de relación con todos los organismos implicados

autoridades locales etcétera si existe una situación de riesgo evidentemente esta es la situación que tenemos

como le he dicho en la medida que se ha detectado un problema en el caso del ozono estamos actuando sobre ello

actuar en otros protocolos trabajaremos también en ello en la medida de que sea conveniente como usted me decía

lo trabajaremos pero lógicamente estamos llevando una gestión que lleva seis meses en fin vamos a intentar avanzar en la medida de las posibilidades del departamento de trabajo que nos permita tener desarrollado

que pueda responder adecuadamente a las necesidades derivadas de situaciones que puedan producirse en caso de emergencia

del aire en euskadi afortunadamente estamos en buena situación ojalá que que hemos conseguido en los últimos tiempos no solamente se mantengan sino que se mejoren es objetivo de este departamento desde luego establecer con rigor un criterio de control de esa calidad del aire y en el caso de que fuera necesario lógicamente adoptar las medidas necesarias para que no haya ningún riesgo para la población y podamos resolver estas situaciones que ojalá que no se han producido y no se produzcan

señor arriola yo le interpelaba

también me ha mencionado cómo es la red

y de alguna manera parte de su información ratifica esa impresión que tenemos desde elkarrekin podemos de que es un tanto complaciente

que mide adecuadamente que cuelga los datos en la página web el informe de ecologistas en acción de dos mil quince dice respecto de la red de calidad del aire de euskadi que en los últimos años han suprimido estaciones en arrigorriaga en portugalete en elorrieta en indautxu en zorroza

de alguna manera lo que están haciendo una cosa que ya nos ha dicho el ayuntamiento de vitoria por escrito como los datos son buenos con el tiempo ni siquiera mediremos es como quien dice hoy no tengo fiebre y vendo el termómetro podemos tener mañana fiebre no entonces es un poco complaciente porque además

han registrado porcentajes de captura de datos para algún contaminante inferiores a los mínimos establecidos por la normativa esto hablando claramente quiere decir que un tercio de las estaciones

los contaminantes para los que están diseñadas un tercio y ya le digo que no tenía intención de hablar sobre la red porque creo que tendremos oportunidad durante la legislatura pero

tenemos que pasar a la otra parte es decir qué hacemos con los datos y me ha citado tres casos por un lado me ha hablado del ozono donde efectivamente existen superaciones

con la estación de abanto por ejemplo la estación de abanto está al lado de petronor lo digo porque no es baladí que esté al lado de petronor entonces en años anteriores había sido conflictiva por los niveles de ozono qué ha sucedido en dos mil quince que ya no ha medido ozono como había problemas pues

como no tenemos termómetro no tenemos fiebre claro

efectivamente exista un protocolo de alertas y avisos y es

y en el ciego por ejemplo en dos mil quince se sobrepasaron los setenta y cinco días de superación de los límites permitidos como en la normativa permite un máximo de setenta y cinco

cada tres años quiere decir que en un solo año en el ciego y en valderejo que no estamos hablando tampoco de sestao en un año han superado los límites que tenían para tres por lo tanto es importante que exista ese protocolo porque a la gente de el ciego y valderejo no es que haya que alarmarla es que estamos obligados a informarles

ha mencionado usted también que no hay problemas con el dióxido de azufre no dice lo mismo

ya se lo he dicho una cosa es no superar los límites legales y otra son los límites de la organización mundial de la salud cinco estaciones de bajo nervión abanto y muskiz también al lado de petronor

superaron en más de tres ocasiones la concentración máxima diaria que la organización mundial de la salud recomienda no exceder

nunca por lo tanto sí tenemos problemas con el dióxido de azufre no los tenemos legales pero sí tenemos un problema de salud con el azufre

que según el gobierno es una empresa limpia e impoluta

episodios pico yo tengo aquí un informe del año noventa y nueve cuando la contaminación era superior

es un informe que se hizo sobre un estudio de mortalidad en el gran bilbao

aumenta significativamente en bilbao entre las personas mayores de setenta años

comprobaron estos investigadores que en los cinco días previos y en los cinco días posteriores al pico se incrementaba la mortalidad de personas mayores de setenta años por lo tanto si usted me reconoce

veinte años después que efectivamente hay momentos en los que se superan los picos de dióxido de nitrógeno en ciertos lugares de euskadi tenemos que concluir que estamos teniendo un incremento de mortalidad si esto es así

lo que es y me gustaría terminar con

que venía a tener una conclusión adicional y es que una reducción moderada de los niveles de partículas finas

insuficiencia cardíaca cada año en estados unidos eskerrik asko becerra jauna denbora pasa zaizu arriola jauna zurea da hitza

señor becerra no se trata de ser complaciente se trata de reconocer lo que tenemos y valorarlo también

como consejero y lo que le puedo decir es que nuestra red de calidad

pero que vienen de muchos sitios para verla y para conocerla y para intentar copiarla en la medida de lo posible también se lo digo

cuando desde otras comunidades se dirigen a euskadi a conocer nuestro sistema de control de calidad del aire cuando nuestras unidades móviles sobre todo las más

son un ejemplo en toda españa y cuando se está trabajando pienso que

en este asunto es verdad que hay problemas

se lo he reconocido y como hemos decretado ese problema que no es nuevo lo que está es protocolizando la actuación y además

la actuación con respecto al ozono le digo también que hemos encargado un estudio específico sobre el comportamiento del ozono

para poder saber mejor cómo actuar para hacer frente a esta situación y mejorar los niveles del mismo en el conjunto del país vasco

en este sentido en la medida que puntualmente se ha podido producir

el año pasado de niveles de dióxido de nitrógeno en bilbao

para trabajar en propuestas que puedan remitir

que pueda además ser exportable también a otros ámbitos municipales en el que pueda haber riesgo de que pueda producirse este tipo de situaciones y que como ve estamos trabajando estamos trabajando creo que con solvencia pero bueno cuando décimos que los datos de la calidad del aire en euskadi son buenos o muy buenos que también hay datos de muy buenos no estamos diciendo

la realidad de los datos derivados de nuestras estaciones de medición en ese sentido lógicamente en esta cuestión como

hay que seguir trabajando hay que seguir en la medida que se detectan necesidades intentando irlas cubriendo hay que mejorar en la medida que

la necesidad de protocolizar actuaciones hacerlo también porque es mejor prevenir en ese sentido

sepa a qué atenerse en el caso de que se produjera situaciones de riesgo o de emergencia y lo iremos haciendo en la medida de que veamos esa necesidad evidenciada por parte de lo que es el área de control del medio ambiente desarrolla su trabajo en el departamento de todas formas yo insisto en que la situación que tenemos en euskadi es una situación que comparativamente es buena en el conjunto del país

el sistema de control que tenemos establecido es un sistema de control eficiente que además no solamente la red propia del gobierno sino la red que está integrada

de las empresas también funciona bien y hay una buena comunicación y un buen control de esa red

y que sin duda como todo en la vida y le decía intentaremos seguir mejorando pero que partimos de una situación que entiendo que es positiva me habla usted de que

total de estaciones que tenemos en la red no se ha reducido de hecho en

referencia que es la zona básicamente del gran bilbao se concentra

de las estaciones son veinticuatro las estaciones que están en el gran bilbao por qué bueno porque lógicamente desde el punto de vista de la ubicación de las mismas

de la normativa y de los técnicos de calidad del aire pues se considera que es una zona que hay que vigilar de forma especial

pero en general le digo que la situación de punto de partida que tenemos

que sin duda como le decía no hay que bajar la guardia

de lo posible mejorar en el futuro eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako

con fecha veinticinco de junio de dos mil quince aprobamos en esta cámara una nueva ley para

ley que recoge los principios y objetivos inspiradores de la ley anterior ley ya derogada de dos mil cinco ley que nos ha permitido avanzar en materia de protección de la calidad del suelo tanto en las actuaciones de particulares como en las actuaciones de las administraciones en general

la reducción de la intervención administrativa simplificación administrativa y principio de no tutela cuando esta no sea necesaria y por otro

la inclusión de estas cuestiones ha provocado la conveniencia de realizar otras modificaciones en la estructura de la ley con el objetivo de mejorar la tramitación

instrumentos y procedimientos en calidad del suelo obligaciones que imponen instrumentos de la política de suelos y régimen sancionador esta ley recoge los aspectos

reguladores para la prevención y corrección de la contaminación del suelo deja para desarrollo reglamentario aquellos aspectos más técnicos o procedimientos

nuevo texto introduce dos novedades en la nueva regulación establece una clasificación de las actividades potencialmente contaminantes del suelo clasificación en función de su potencial de contaminación y que permite determinar las obligaciones y medidas correctoras ajustadas

con el objetivo de agilizar la intervención administrativa en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo

es validar la adecuación del suelo para el uso propuesto

más sencillo que tiene por finalidad validar la actitud del suelo exclusivamente para uso industrial caso en el que no será

total que estamos en un avance del nuevo texto normativo que se queda en agua de borrajas si no elaboramos el correspondiente desarrollo reglamentario y así por ejemplo el capítulo quinto que recoge las cuestiones generales relativas a los procedimientos administrativos en materia de calidad del suelo

el desarrollo reglamentario por ejemplo el artículo veintinueve nos habla de las normas de procedimiento en materia de calidad del suelo

a los distintos procedimientos en materia de calidad del suelo ahí estamos es una de las cuestiones que nosotros queremos que nos aclare cómo va el desarrollo de esta ley porque ya hace dos años de su aprobación y nos gustaría saber cuál es la realidad sabemos que usted acaba de llegar y efectivamente los

se regulará tanto los procedimientos para declarar la calidad del suelo como el procedimiento para acreditar la posterior recuperación

se establecerán los instrumentos de colaboración interinstitucional necesarios para que los ayuntamientos tengan conocimiento de la finalidad de los plazos de resolución de los expedientes

pero es aquellos terrenos que corresponden a dos ayuntamientos distintos y tenemos

donde está teniendo una problemática especial

instrumento de conocer y controlar la calidad del suelo el artículo

de los objetivos situaciones que pueden verse afectados por la contaminación del suelo esto también se determinará reglamentariamente

del suelo que concluirá con un informe y que el contenido de esos informes se especificará reglamentariamente

de suelo de las actividades y categorías es decir que esta ley

muy potente y yo coincido que no es fácil hacerlo pero la realidad en este momento es que hay una queja amplia generalizada de aquellos promotores de actividades para desarrollar en los polígonos industriales de la comunidad autónoma vasca por la tardanza y demora en responder y dar salida a los expedientes sobre contaminación de los suelos la queja viene distintos ámbitos de sindicatos empresariales desde empresas concretas que llaman por qué no saben qué hacer que no saben dónde está su expediente que necesitan una respuesta para avanzar

entonces nos gustaría saber qué datos tiene señor consejero sobre esta situación de demora en la respuesta a los expedientes que solicitan los promotores qué plazos estima el gobierno para aprobar los reglamentos de esta ley especialmente los

si algo se insistía es que bueno vamos a agilizar esos procedimientos que son largos y resulta que lo que tenemos es en este momento que no sabemos exactamente

pero lo que tenemos es un atasco y una queja bastante amplia por lo tanto señor consejero el objeto de esta interpelación es conocer cuál es la realidad conocer cuál es el desarrollo reglamentario de la ley y conocer cuáles son los motivos o si tienen usted datos de los motivos de esta demora en la respuesta a los expedientes de solicitudes

suelos contaminados la contaminación de los suelos industriales y bueno si ustedes están teniendo también esta sensación de queja de demora

y tratar de saber si están buscando soluciones para esta situación muchas gracias

gracias señora presidenta señora lópez de ocariz usted me hace

si es propósito del gobierno desarrollar los reglamentos de la ley cuatro barra dos mil quince de veinticinco de junio para la prevención y corrección de la contaminación del suelo

respuesta clara y directa sí y le digo que con mi respuesta no descubro nada nuevo

puesta en conocimiento en general de la ciudadanía y todas las administraciones y se ha fijado como parte del desarrollo normativo a acometer por este departamento en varias ocasiones ya

las tareas de desarrollo legislativo que se había marcado el departamento este decreto entre dichas tareas el tres de mayo del diecisiete se publicó la orden del consejero de medio ambiente planificación territorial y vivienda en el que se aprueba la planificación normativa anual del departamento y en su anexo uno se incluye de forma expresa el decreto de desarrollo de la ley

y con fecha nueve de mayo del diecisiete por acuerdo del consejo de gobierno se aprobó y publicó el plan anual normativo del gobierno previsto para dos mil diecisiete y en el mismo se incluye también el decreto sobre suelos contaminados

entiendo que está acreditada desde hace ya unos meses la respuesta positiva a la pregunta planteada no obstante como comprenderá el desarrollo reglamentario de una ley sobre todo de unas normas que tienen especial trascendencia sobre la ciudadanía y las empresas

parcial debe realizarse desde el rigor en las actuaciones administrativas lo que requiere un tiempo prudencial de reflexión y análisis tener en cuenta la experiencia recogida en estos dos últimos años desde la entrada en vigor de la ley

de los agentes del sector usted en su argumentación hace referencia a la dualidad de procedimientos en materia de calidad de suelo y a luz de la necesidad de desarrollar reglamentariamente el capítulo quinto de la ley

efectivamente ha hecho referencia a otras cuestiones que se recogen en la ley y que

concluye con la declaración de calidad del suelo y que concluye con la declaración de actitud

y además en la ley de dos mil quince se introduce también todo un capítulo de exenciones para simplificar la aplicación de la normativa queda bastante clara la ley y el desarrollo procedimental

la remisión reglamentaria no es tanto sobre el procedimiento como usted indica si no sobre las herramientas que efectivamente permiten concluir en un pronunciamiento administrativo basado como no puedo ser de otra manera en la seguridad jurídica centrarse solamente en el desarrollo del capítulo quinto pues no sería

efectivamente usted aquí ha recordado que hay una serie de artículos que

requieren desarrollo reglamentario y que van a formar parte del reglamento del desarrollo de la ley y expresamente

sobre el alcance contenido y periodicidad de los informes de situación del suelo

el artículo once sobre el contenido mínimo de los análisis de riesgos los artículos doce y trece sobre el contenido de los estudios de alternativas y planes de recuperación de suelos contaminados y planes de excavación creativa de emplazamientos inventariados el artículo catorce sobre la investigación del estado final del suelo

relativo a las actualizaciones periódicas para el conocimiento de la situación del suelo el artículo veinticinco sobre el umbral de excavación o relación con los supuestos de exención de los procedimientos de declaración en materia de calidad de suelo y los artículos treinta y siete y treinta y ocho sobre el contenido mínimo

todo lo anterior además supone la necesidad de elaborar anexos técnicos que permitan la mejor aplicación de la nueva normativa bien de acuerdo con lo que le he comentado qué es lo que ha hecho el departamento hasta la fecha de hoy

de dos mil quince pues bien ya en dos mil dieciséis se iniciaron parte del departamento las labores para ir

en aras a la mejor aplicación de la ley y a la resolución de dudas se han ido publicando desde el departamento distintas notas técnicas

evitando así cualquier vació legal y promoviendo

a propósito tengo que decirle que la cifra promedio de entrada de expedientes en el área de suelos contaminados desde enero de dos mil diecisiete asciende a setenta y cinco

cuando lo habitual en base a las estadísticas históricas del departamento

expedientes mensuales unas de las dificultades que entraña este decreto es el alto nivel técnico que requiere su redacción y por eso el departamento está siendo exhaustivo desde el punto de vista del examen técnico y administrativo

después de hacer la oportuna valoración se decidió avanzar por un lado con el articulado y por otro con los anexos buscando la mayor coherencia entre ambos pero estableciendo un componente técnico más amplio para el caso de los anexos a día de hoy está prácticamente finalizada la redacción del articulado

avanzada una vez que tengamos el texto completo el borrador de decreto

distintos agentes implicados en la materia con el objetivo de generar en la medida de lo posible el mayor consenso y de disponer también de distintas perspectivas que enriquezcan el texto final

del sector se recabará lógicamente el resto de dictámenes preceptivos

que los trámites y la evaluación de informes y dictámenes preceptivos de los diferentes

de forma que podamos cumplir con el objetivo de que este decreto se apruebe por el consejo de gobierno

que están en ello y que me hablan de final de año para que este decreto esté publicado

que me parece muy importante el aumento del número de expedientes que entran en el departamento en esta área y casi me habla que se ha duplicado el número de expedientes

señor consejero estimo que también habrán ampliado los servicios técnicos para atender esta demanda porque lógicamente

lo que nos trasladan desde distintos ámbitos como le he dicho es una cierta preocupación

mucho tiempo esperando a que se resuelva su expediente y que están en una situación muy crítica por lo tanto señor consejero creo que tenemos que estar en condiciones de dar respuesta inmediata no saltándonos los procedimiento técnicos pero estos expedientes no pueden estar archivados ahí esperando a que

detrás de esto hay proyectos empresariales muy importantes hay desarrollos que pueden verse afectados por la tardanza en resolver estos expediente y la pregunta como le decía es

el desarrollo de la ley es lo que provoca esta

de los expedientes si hay otras causas cómo piensan regularizar esta situación de acumulación de expedientes supongo que a ustedes les ha llegado como a nosotros esta preocupación desde los sectores industriales tanto desde organizaciones industriales como a título individual

de esto va a depender que el proyecto siga adelante o no del periodo que ustedes utilicen para responder por lo tanto yo creo que nuestra obligación es facilitar

hagan lo más ágiles posibles y no perjudicar

que están proyectados para nuestro territorio y que este parón administrativo

a que utilicen todos los medios que estén a su alcance para

de alguna manera almacenados y sin respuesta en tiempo y forma como correspondería nada más muchas gracias

bueno por una parte señora ocariz ve usted que en estos meses de gestión que llevamos en el departamento

reglamentario de esta ley que hemos avanzado mucho en el trabajo interno y que en ese sentido

podamos cumplir con el objetivo de aprobar este decreto

en lo que depende del trabajo interno como le decía está muy avanzado

que la aprobación de un decreto es farragoso de un punto de vista de los informes que ya no dependen directamente

pero vamos a intentar que sea posible conseguir ese objetivo porque sí que entiendo que es necesario que se pueda producir este desarrollo reglamentario y que podamos hacerlo en los plazos más breves posibles

en el mismo y seguridad que es lo importante en estas cuestiones que son además sensibles

de los ciudadanos no me consta que haya retrasos mayores en este tiempo de gestión

es verdad como le decía que el número de expedientes presentados se ha incrementado sustancialmente

la reactivación económica que estamos teniendo en los últimos tiempos y que puede hacer que

de lo que supone una noticia que puede permitir

y lógicamente desde el departamento la instrucción es bueno pues ser lo más eficientes desde el punto de vista de la respuesta

en el tiempo la respuesta a estos expedientes en la medida que supone la tramitación administrativa o parte del departamento de medioambiente es cierto que la propia ley

se preveía una dotación necesaria para el desarrollo de este servicio y se

trece puestos de trabajo estamos sensiblemente por debajo de

prevista en la ley necesitaríamos ocho más para poder cubrir pero también estamos en un momento en que las plantillas han estado congeladas y no precisamente por voluntad del gobierno sino por imperativo legal

del gobierno de españa y que han afectado al conjunto de las administraciones públicas y que han supuesto congelación de plantillas por lo tanto tampoco se puede pedir

que tener mayor plantilla que poder en ese sentido poder responder mucho más ágilmente a las demandas de las empresas y de los ciudadanos

decirme que hay quejas por parte de las empresas en el sentido de que se retrasa su expediente por parte de la tramitación que hace el departamento de medioambiente

y no tenga usted ninguna duda de que en la medida de las posibilidades legales lo pelearé y también lo haré con función pública para que podamos tener la mejor dotación de medios humanos que nos puedan permitir responder adecuadamente a las necesidades derivadas

y de las administraciones públicas también y de los ciudadanos en este país pero es lo que tenemos entre manos y con lo entre manos tenemos que responder lo cierto es que no me consta una

en los últimos tiempos probablemente esto es una situación histórica histórica que no es nueva sino que viene un poco acumulada del tiempo y que en la medida de las posibilidades intentaremos resolver ojalá tengamos también en ese sentido

cuantificar las plantillas necesarias para hacer frente a las necesidades que tenemos en cada uno de los departamentos y que eso sea así de cara a futuro

pues también se liberalice un poco y se deje actuar a las administraciones

es el último pleno de control en este periodo de sesiones y durante todos estos meses pasados hemos asistido a declaraciones cruzadas

que habría un diagnóstico común y que evidentemente se presentaría una reforma si es que se presentaba en el mes de septiembre para que pudiera estar aprobada

para el año que viene hemos asistido a cómo las tres diputaciones han hecho una especie de balance de la última reforma fiscal yo el balance que le tengo que decir que me ha parecido cuando menos pobre vamos a dejarlo

y segundo porque ni siquiera se ha tenido en cuenta sabiendo que desde el mes de enero la recaudación se estaba incrementando mucho durante este ejercicio

que se ha incrementado la recaudación en más del diez por ciento y que prácticamente corresponde al impuesto de sociedades cuando lo que se ha estado hablando es del impuesto de sociedades durante todos estos meses pasado pues digamos que echamos en falta

alguna valoración sobre lo que está pasando estos meses con el impuesto de sociedades y también nos hubiera gustado que las diputaciones hubieran hecho la diferenciación entre la recaudación

y la recaudación por la normativa derivada de las medidas del señor montoro

y en cualquier caso entendemos que habrá que poner en común cada una de los tres digamos conclusiones de las diputaciones con el gobierno vasco para llegar a alguna conclusión común y que supongo que se trasladará al oct y por eso tenemos nuestra pregunta

vamos a tener un diagnóstico común o más o menos por dónde pueden ir los tiros de esa supuesta reforma fiscal eskerrik asko

como usted bien sabe hace escasas semanas ante una pregunta del señor bollain

la evaluación conjunta que usted demanda de la reforma fiscal del año

y también lo dije entonces respetando los ámbitos competenciales como no puede ser de otra manera

de que las propias diputaciones ya habían avanzado algunos datos de interés también como usted ha hecho referencia

en mi opinión hoy esta situación no ha cambiado sustancialmente y la información avanzada está siendo estudiada y valorada en los términos en que debe hacerse y ello por dos motivos en primer lugar porque un diagnóstico

sino para tomar decisiones de cara a nuevos ajustes

y en segundo lugar porque en nada ha cambiado la visión de este consejero y de este gobierno al que represento en relación al modelo tributario vasco y a la necesidad de acrecer o incrementar ingresos del sistema tributario

para que exista una suficiencia financiera para la prestación de servicios al margen también que es importante que sirva el sistema tributario para impulsar la actividad económica tenga por lo tanto señor damborenea la seguridad de que más pronto que tarde se van a suceder las evaluaciones de la reforma fiscal

a las siguiente modificaciones cambios o lo que sea que haya que hacer en todo caso eskerrik asko eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta señor consejero crecer en ingresos es lo que está ocurriendo en más del diez por ciento es decir

aunque no fuera el diez por ciento fuese el cinco por ciento o el seis por ciento más

el señor consejero me reconocerá que no conocemos a nadie que gane el cinco por ciento más o el seis por ciento más en la situación económica en la que estamos y digo nadie ni empresas ni nadie es decir yo creo que tener un incremento de recaudación por encima del cinco o del seis por ciento me parece que es bastante

le quiero recordar porque usted y yo firmamos

hace pocos meses un acuerdo y en esta materia acordamos usted y yo y firmamos el gobierno y nosotros que cualquier planteamiento de reforma fiscal deberá contemplar un amplio acuerdo que no traslade a las rentas medias y bajar

y favorezca la competitividad de las empresas vascas especialmente de las microempresas pequeñas y medianas y favorezca el ahorro y la inversión esto es lo que algunos entienden por hacer atractivo el país para que vengan inversiones y se cree empleo

y desde luego confiamos en que este gobierno cumpla con lo que firmamos en su momento eskerrik asko damborenea jauna azpiazu jauna zurea da hitza

señor damborenea yo no puedo decir más de lo que le he dicho ya creo que es tiempo de no precipitarse ni a la hora de avanzar datos ni a la hora de tomar decisiones efectivamente la declaración está subiendo hay muchos efectos que juegan esa declaración las deducciones del año pasado creo que hay que esperar a que

tributariamente para obtener recursos y no saber qué hacer no no nosotros estamos dentro de los márgenes evidentemente de la sensatez y estamos pensando en la financiación de las políticas

que le he comentado y evidentemente claro que respetamos yo mire le voy a citar el acuerdo que firmamos decía la fiscalidad debe tener dos objetivos complementarios por un lado obtener los recursos fiscales necesarios para financiar los gastos e inversiones del gobierno vasco diputaciones y ayuntamientos y en eso estamos y además favorecer el crecimiento económico la inversión la creación de empleo estable y de calidad

muy preparada pueda desarrollar su proyecto de vida en el país vasco por ello seguía

una merma de sus ingresos y favorezca a la competitividad de las empresas vascas especialmente de las microempresas

eso decía el acuerdo pero dicho esto y con la misma rotundidad le diré que tampoco olvido

obliga a que impulsar desde el órgano de coordinación tributaria

de la normativa fiscal precisa para incentivar

y para salvaguardar las políticas sociales y los servicios públicos esenciales en estos parámetros de actuación futura implementará este gobierno su visión fiscal cumpliremos estrictamente con los compromisos señor damborenea no tenga ninguna duda en ese sentido y espero que todos

ez zen nahikoa inolaz ere si nos situamos en los citados

hay que tener en cuenta que la lista de candidatos y candidatas para las sustituciones

por estas fechas pero como digo en el momento de comenzar a realizar las llamadas tan solo veinte de esas personas se mostraron dispuestas a aceptar la plaza que se le ofertaba

pero resulta complicado prever una situación como esa desde luego no es nada habitual

berriro diot nahiz eta bostehun pertsona baino gehiagoko lan poltsa izan la disponibilidad de las personas se conoce en el momento en que se realizan las llamadas

además este año ha sido mucho mayor el número de sustituciones a realizar

el aumento del número de sustituciones a realizar y la disponibilidad de tan solo veinte personas entre una lista de más de quinientos candidatos apuntados en citada lista sarritan

esto es cuatro días antes de la apertura de las listas dos de los sindicatos responden al correo

les sorprendió que eso ocurriera porque repito no es habitual que eso ocurra

y en él entre otras cuestiones se solicitaba lo siguiente zerrendak irekitzea eta

por tanto la solicitud del sindicato mayoritario coincidía con la decisión que finalmente adoptó la dirección del consorcio

también solicitaba la apertura inmediata de las listas para poder acometer las sustituciones y el sindicato ela no contestó beraz

más adelante como todos los años durante el proceso de baremación los casi cuatro mil candidatos y candidatas que finalmente se han inscrito en la lista serán baremados

en función de sus méritos en este caso que nos ocupa no daba tiempo a llevar a cabo un proceso de baremación y la dirección debía garantizar las sustituciones

desde la dirección del consorcio son conscientes y nosotros también de la situación generada y lo sentimos realmente es una situación inusual y con

lo primero en lo que pensaron desde el partzuergo era en dar una respuesta a la necesidad generada

consejero de salud compañeros parlamentarios compañeras parlamentarias egun on guztioi

hace eco en esta interpelación de un problema que ha salido a la prensa

acerca de la necesidad de la propuesta de que exista en el área de

soporte vital avanzado con médico en nuestra opinión este problema es la punta del iceberg de un problema generalizado de la red de transporte sanitario de urgencias de euskadi que tarde o temprano vamos a tener que abordar

en esta legislatura en nuestra opinión

porque lo haya planteado esk o porque lo haya planteado

es un elemento de oportunidad de mejora las críticas al departamento de salud de la gente que defendemos la sanidad pública vasca y consideramos la salud un derecho

señor consejero lo sabe perfectamente que conoce los procesos de gestión y de dirección

nunca elkarrekin podemos estaríamos en este atril hablando alrededor de un recurso necesario como este

o fuese un tema inadecuado bajo el punto de vista de la dimensión financiera y de recursos que en este momento nuestra organización de emergencias tiene en la comarca bidasoa

emergencias osakidetza es una organización que tiene como misión la asistencia sanitaria de carácter urgente en el ámbito extrahospitalario garantizando cuando se necesite la atención veinticuatro horas

traslada enfermos de un hospital a otro como es el caso que nos ocupa del hospital de bidasoa al hospital universitario donostia cómo funcionan estas cuestiones bueno

reciben las llamadas que precisan asistencia sanitaria tanto vía ciento doce como vía teléfonos de osakidetza y tras recibir el aviso del centro coordinador habitualmente atendido por un profesional sanitario

y moviliza el recurso adecuado y atiende el problema qué recursos tenemos en la red sanitaria de transporte urgente

de acuerdo con el tipo de servicio que se vaya a hacer tenemos las llamadas soportes vitales avanzados por médico problemas graves politraumatizados gente que no necesita

amplia de tiempo y que nos estamos jugando la vida del paciente tenemos soportes vitales básicos con técnicos sanitarios que de acuerdo con una gravedad menor del problema atienden a los pacientes de acuerdo con la movilización que hace de ello el gestor

amplia de ambulancias concertadas que lo que hacen es trasladar enfermos de diálisis a domicilio de rehabilitación a domicilio

movilizan estos recursos el profesional que atiende el teléfono de acuerdo con el

la gravedad del paciente no quiero esconder que dentro de los problemas que tenemos en

los tiempos de atención en los problemas graves tienen que ver con la capacidad de supervivencia las últimas investigaciones que he tenido acceso hablan de lo que se llama corazón tiempo o cerebro tiempo para hablar

asuntos que tenemos bajo el punto de vista de las ciencias de la salud baterías terapéuticas suficientemente

pero es el tiempo de atención quien determina la capacidad de supervivencia o de lesiones irreversibles bien el incidente se gestiona así y qué tenemos en gipuzkoa bueno tenemos cuatro unidades de soporte vital avanzado con médico

tolosa y arrasate dos unidades de soporte vital avanzado con enfermería

y veinte unidades de soporte vital básico integradas normalmente por técnicos sanitarios aparte de eso después de las cinco como sabéis

médicos a domicilio y los traslados correspondientes

qué tenemos en la comarca bidasoa en la comarca bidasoa hay dos unidades de soporte vital básico

entonces el departamento hizo una propuesta de crear un soporte vital avanzado

entonces los trabajadores y las trabajadoras de emergencias

las plataformas ciudadanas correspondientes y los

pues no estuvieron de acuerdo no ya con que el recurso sea suficiente para el conjunto de problemas que aborda la comarca bidasoa sino

inmediatamente establecieron una reunión con los alcaldes al ver la repercusión mediática de un problema que no tenía que haber tenido repercusión mediática

no podemos analizar cada cosa al margen porque todo funciona de forma coordinada y sincronizada entonces los viceconsejeros

tuvieron esa reunión analizaron el tema y quedaron para estudiarlo bueno eso sí ahí el consejero es muy hábil porque están hablando de una unidad de soporte

y ofrecía un helicóptero es una habilidad que tú pidas una cosa

bueno esto es una anécdota las recomendaciones a nivel internacional es que hay una unidad de soporte vital básico

que una unidad de soporte vital avanzado para ciento veinte mil habitantes aproximadamente la ambulancia que cubre

la comarca de bidasoa está en donostia y abarca

según el censo del dos mil dieciséis pero no solamente eso sino que además de tener esos habitantes con una distancia de más de cuarenta kilómetros

pues además tiene las siguientes actividades trasladan enfermos graves en este caso del hospital bidasoa al hospital universitario de donostia cuando digo graves quiero decir ictus politraumatizados problemas de neurocirugía también partos que no hay en bidasoa

y también pediatría problemas graves de niños y niñas porque hasta las tres no hay pediatra además de esas actividades esa ambulancia para atender los problemas

tiene toda la línea de accidentes y politraumatizados en una de las zonas más densas de accidentes por el carácter fronterizo

además de los problemas graves de traslados interhospitalarios hay dos convenios interesantes que nuestro departamento asume uno es el llamado convenio transfronterizo donde los ciudadanos franceses de la zona se les traslada a sus hospitales de referencia

y además tenemos acuerdos con la parte navarra que está lindante que son unos diez mil habitantes aproximadamente que son la zona

atendemos pues navarra la parte vasco francesa iparralde atendemos

y atendemos los problemas graves que se detectan la unidad de soporte

no da para eso no solamente no cumplen los criterios

sino que no es posible si queremos claro que los isócronas que las distancias y los tiempos sean adecuados insisto en el tema

son los problemas esenciales en la mortalidad de estas dos patologías

aun más los médicos de las medicalizadas del soporte vital

osatuz este conjunto de recursos está distribuido por toda la comunidad y está distribuido como conoce usted bien y compartimos señor uria con criterios de eficacia

tiene presentes fundamentalmente los riesgos las características orográficas y sociológicas

allí mismo no en todas las zonas de euskadi y no me estoy refiriendo precisamente a tolosa hay un hospital en las comarcas y además

y permite una respuesta adecuada a la demanda en materia de atención traslados en urgencias y emergencias sanitarias

de su grupo por el transporte sanitario urgente de la comarca bidasoa máxime cuando este año en el presupuesto presentado en el mes

había una enmienda al presupuesto del departamento de salud con una cantidad para mejorar la dotación del transporte sanitario urgente en la comarca bidasoa no recuerdo exactamente cuál fue a esa enmienda el sentido del voto de su grupo ahora en el segundo turno

recordar pero bueno había una enmienda presentada debatida y aprobada en esta cámara para mejorar la dotación del transporte sanitario urgente en la comarca del bidasoa supongo que este hecho responde por sí mismo a la pregunta y no deja lugar a dudas sobre la voluntad el departamento de salud del gobierno vasco de mejorar la dotación de recursos en esa comarca

y el código infarto comparto con usted la preocupación

de que en la comparativa estatal y europea

y al código infarto son de los mejores y entran dentro

como de cardiología y concretamente en el código infarto como usted también conoce la red bihotzez implementada por el departamento de salud

ha tenido un trabajo intenso es verdad que planteamos una modificación de la situación del transporte sanitario en bidasoa que despertó inquietud en los ayuntamientos por eso nos reunimos la pasada semana con los alcaldes y no se me van a caer los anillos cuando le digo que le di la razón que realmente

que hay de soporte básico sino incrementar uno de avanzado como así se lo transmitimos a los alcaldes en cualquier caso y aprovechando su interpelación dedicaré unos minutos también a explicar las diferentes modalidades de transporte sanitario sobre las que usted ha incidido

distribuidos en los tres territorios que trabajan en red

y son coordinados desde emergencias por profesionales médicos

todos los días del año para dar la mejor respuesta en función de los recursos disponibles y la situación en cada momento la red está compuesta por los puntos de atención continuada

de soporte vital básico las unidades de soporte vital avanzado tanto con médico como una enfermera y también el helicóptero de transporte sanitario que tiene la comunidad el transporte sanitario por carretera está regulado por el real decreto ochocientos treinta y seis barra dos mil doce

y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario terrestre y se define como ambulancias no asistenciales

y ambulancias asistenciales cuya principal característica es que permiten la asistencia sanitaria en ruta estas últimas dentro de ellas hay varias categorías las de soporte vital básico y las de soporte vital avanzado las de soporte vital avanzado clasificadas como de clase cien como usted muy bien ha dicho además

en emergencias sanitarias llevan un médico o médica y o una enfermero o enfermera mintzagai dituzun baliabide zehatzei eta gune jakinari

osoan voy a recordar los recursos con los que cuenta gipuzkoa como bien ha dicho usted actualmente en donostia contamos con dos unidades de soporte vital avanzado una con médico y otra con enfermera además de cuatro unidades de soporte vital básico

que se refuerza con un recurso extraordinario durante los meses de verano y contamos además

tolosa y arrasate y disponemos de dieciséis unidades de soporte vital básico en andoain arrasate

en resumen gipuzkoa dispone de seis unidades de soporte vital avanzado veinte unidades de soporte vital básico y los refuerzos que se ponen en verano para atender a una población que según el eustat es de setecientos diez mil seiscientos noventa y nueve habitantes

de araba y gipuzkoa pero no se los voy a detallar localidad a localidad pero sí le voy a decir

en su capital vitoria gasteiz dispone de cuatro unidades de soporte vital avanzado

además también de los refuerzos que ponemos en verano fundamentalmente en rioja alavesa

dispone de once unidades de soporte vital avanzado y veinticinco unidades de soporte vital básico lo que si hace usted el análisis que estoy seguro

verá como no es precisamente el territorio de gipuzkoa menos recursos en transporte sanitario y los recursos muchos o pocos están bastante equilibrados y dando una respuesta satisfactoria

no quiero caer en la simplificación de una realidad que en su conjunto

desde una perspectiva global además es importante tener presente que la gestión de la emergencia siempre dinámica no existen recursos de un área

la gestión desde los centros de coordinación se beneficia de los movimientos de las unidades en formato preventivo para cubrir las zonas

ocupados además de los recursos disponemos de un helicóptero que tiene una buena accesibilidad en tiempos

el tamaño de euskadi pero efectivamente hay alguna zona

y es nuestro objetivo también poder disponer de ese recurso ha hecho usted mención a los acuerdos transfronterizos ha hecho usted mención a la autopista

mire desde el año dos mil cinco no se han modificado los recursos de la comarca bidasoa por lo tanto

han pasado muchas personas analizando el sistema y por lo tanto contando con lo que hay y contando con los riesgos

nosotros y nuestro grupo parlamentario de que el departamento de salud haya escuchado tanto las críticas propuestas sugerencias del sindicato

alcaldes de la zona en concreto de irun señor santano y hondarribia

cómo me alegro de que hayan tomado la decisión de efectivamente ubicar colocar

en la comarca bidasoa son buenas noticias

se percibe en la población en las instituciones y en los trabajadores de emergencia de la zona que eso es necesario

la ambulancia de soporte vital avanzado de donostia atiende

y el resto de las tres ambulancias de soporte vital avanzado con médico que están ubicadas en elgoibar tolosa y arrasate atienden a doscientos noventa mil lógicamente el componente de dispersión geográfica es fundamental para ubicar nuestros recursos y buscar su eficiencia permítame muy brevemente algunas reflexiones por qué le planteo y una vez solucionado el tema que van a más pronto que tarde enhorabuena las reflexiones de por qué digo que esto es la punta del iceberg y por qué nuestro grupo político está preocupado antes de empezar las sesiones yo ya le comenté señor consejero que tenemos un problema con el transporte público en euskadi solamente recordarles

primero son continuos los conflictos laborales en el sector del transporte público de euskadi en los últimos años continuos dos

concertado y propio y de su trabajo es obvia tres no hablo de auditorías de instalaciones hablo de auditoría de funcionalidad de tiempos de

tres la insuficiente dimensión financiera para atender los problemas de salud y la demanda de los pacientes en el terreno de la urgencia en el conjunto de los tres territorios es evidente cuatro la fragmentación de empresas y de representación sindical en el sector privado concertado complica los procesos de negociación del sector no crea que

por ejemplo de lo que estamos hablando solamente en gipuzkoa de las cuatro

servicio vital avanzado dos son privadas y dos son públicas cinco

un diagnóstico del sector propio y concertado de la emergencia y de la red de ambulancias para adecuar los recursos

es importante es necesario en nuestra opinión el mejor escenario es una empresa pública de transporte sanitario

con controles con protocolos con evaluación de su funcionamiento que se podía llamar euskal osasun garraioa que supere estos problemas pero vamos a empezar por poner la ambulancia de soporte vital avanzado con médico en bidasoa y seguiremos hablando porque la legislatura es larga señor consejero le auguro con todos mis respetos se lo digo que como no

concertados y propios de la red de emergencia osakidetza en su conjunto va no

a tener disfuncionalidades mucho más de lo que nos podemos imaginar la emergencia y la red de transporte son

nos va a crear problemas y va a desprestigiar sistemas que funcionan a veces bien y a veces regular y además a veces van a crear preocupación en nuestra población porque como bien dicen los alcaldes de la zona no se juegan con estos temas

de cerebro tiempo y efectivamente conozco las comparaciones estatales e internacionales no estamos mal lo cual no quiere decir

tiene la voluntad y van a mejorar los recursos de emergencias en la comarca bidasoaldea además de mantener los recursos de soporte vital básico con los que se cuenta actualmente es nuestra intención implementar nuevos recursos y tratar de sacar mayor partido de los residentes

realizar un análisis global de la situación y de las necesidades pero sin incurrir en el error de analizar

además se debe tener en cuenta tanto el transporte sanitario por carretera como el aéreo y no es un conejo en la chistera es una realidad hay un helicóptero mejora determinados tiempos

y estamos obligados a utilizarlo así analizados estos aspectos en su conjunto consideramos que el helicóptero de emergencias de osakidetza está

debemos facilitar el que en una zona próxima al hospital pueda aterrizar por lo tanto le voy a resumir

en la comarca bidasoa se mantendrán los recursos de soporte vital básico actuales

no le he oído a usted la reflexión de qué es lo que puede hacer un médico que no puede hacer una enfermera en transporte sanitario no le he oído esa reflexión en cualquier caso no tengo una varita por lo tanto

o con médico en función del análisis que determinemos y también esperamos poder disponer de un helipuerto para su uso por el helicóptero de emergencias

de la calidad del transporte sanitario

que me sorprende usted ha sido miembro de la delegación territorial

sabe exactamente qué se hace respecto al transporte sanitario y sabe que el transporte sanitario no lo controla el consejero no está para eso pero sí es controlado por

funcionario adscrito al departamento de salud que periódicamente hace un informe de cada uno de los servicios

no me ha respondido hizo alguna enmienda elkarrekin podemos al presupuesto del dos mil diecisiete de este gobierno sobre el transporte sanitario urgente en esta comunidad en cualquier caso tendrá usted posibilidades de hacerlo el año que viene y yo también lo debatiré lo debatiré ha apostado usted por una empresa pública de transporte sanitario mire

porque es que no hay ninguna en el estado y si mira usted

hacia el sur pues verá que la situación del transporte

y el modelo de calidad de funcionamiento del transporte sanitario no depende de que sea público o concertado y en esta comunidad y en el resto del estado esta prestación ha sido concertada pero en cualquier caso dado que ustedes son un partido de ámbito estatal y apoyan gobiernos en otras comunidades pues me puede usted

se ha publificado y yo gustosamente mandaré a los técnicos del departamento de salud a ver los resultados los costes y

del servicio y en cualquier caso coincido con usted en que el transporte sanitario es una prestación muy importante ha mejorado notablemente desde los centros coordinadores ha ido mejorando implementándose recursos se han ido haciendo mayor capacitación en esos recursos si mira usted hacia atrás

ha ido mejorando puede ser que despacio pero ha ido mejorando se ha ido incorporando el helicóptero un recurso muy costoso pero que para poblaciones

que las tenemos tenemos ondarroa a una distancia del centro hospitalario más próximo

que tiene un hospital comarcal allí pero en cualquier caso tenemos la firme voluntad de tener un transporte sanitario de calidad y de mejorar los recursos

gestiona una residencia municipal con una cocina colectiva en dos mil nueve se planteó utilizar esa cocina colectiva para dar servicio al comedor de la escuela municipal que

le enseño una foto está situada apenas a cinco metros de distancia mi pregunta es cuáles son las razones por las que desde dos mil catorce su departamento impide
que esta cocina dé servicio a ambos comedores eskerrik asko

a la residencia de ancianos pero son edificios independientes y hay una normativa

sean instalaciones públicas o sean instalaciones privadas la normativa es igual para todos y la razón por la que hasta la fecha no se ha permitido es muy sencilla

de este consejero ni de ningún alto cargo político

simplemente porque los técnicos del departamento de salud hasta el momento han considerado que la cocina de la residencia municipal de orduña no

sin las modificaciones precisas en la cocina para la seguridad alimentaria de la residencia de ancianos y de los niños en todo caso yo creo que usted conoce que se está trabajando con el departamento de desarrollo económico e infraestructuras con el de educación con el ayuntamiento de orduña

a fin de dar la mejor solución posible a esta situación que compartimos con usted queremos darle seguridad queremos respetar la normativa
y queremos que se haga eskerrik asko darpón jauna

señor consejero ha dicho usted que desea que se cumpla la normativa tendría que decir cuál es esa normativa porque el problema que tiene ahora mismo el ayuntamiento de orduña es que le han exigido hasta tres normativas diferentes

en dos mil nueve su departamento le comunicó al ayuntamiento de orduña que debido a que los dos comedores no estaban situados en el mismo edificio debían cumplir los requisitos correspondientes a una cocina central así lo hicieron el ayuntamiento encargó el proyecto

este informe favorable de su departamento favorable cocina central favorable dos mil once

la cocina ya estaría legalmente habilitada para funcionar pero fueron prudentes en el ayuntamiento y cuando en noviembre de dos mil catorce se decidieron a dar servicio a la escuela

ahí empezó su calvario administrativo desde entonces no se hizo más que poner pegas y exigir nuevas condiciones cuando en diciembre de este año pasado el ayuntamiento

va a ver si esta todo en orden su departamento decide cambiarles las reglas de juego ustedes sabrán por qué yo no digo que sea usted personalmente obviamente y les dicen que ahora tienen que cumplir las normas de una cocina para servicios colectivos es decir de una cocina de catering claro a una cocina de ochenta y cinco metros cuadrados para elaborar doscientos menús le exigen

y claro no tiene las dimensiones suficientes y ahora les dicen que no es suficientemente grande pero la cuestión vuelvo a enseñarle la foto ustedes le han exigido como condición

la traslade en cinco metros y la calienten cinco metros más allá y le han exigido además un vehículo de transporte porque claro como le han exigido que sea una cocina de catering un vehículo de transporte para pasar esto cinco metros aun así

bien pues ustedes en abril le denegaron la prórroga y en mayo les han denegado la autorización

y que yo sepa todavía no se definen así las residencias de ancianos

porque después de todo este historial de despropósitos jurídicos y administrativos este tema ha dejado de ser un asunto administrativo para ser un problema político porque ahora mismo tienen ustedes

al ararteko que observa con estupor como este es un caso de manual de maltrato administrativo al departamento de agricultura que consiguió financiación europea para el proyecto

los fondos al departamento de educación que incluyó este comedor en el proyecto piloto de comedores escolares y ve que esto no sale adelante y a decenas de familias que ayer mismo fueron al centro comarcal de salud pública de llodio

a un simple comedor escolar se le han cambiado hasta tres veces la normativa de aplicación y ahora mismo no saben a qué quedarse muchas gracias eskerrik asko becerra jauna

señor becerra entenderá por razones obvias que

en el año dos mil nueve y dos mil once no sé lo que pudo ocurrir lo preguntaré en el departamento lo preguntaré vuelvo a repetirle si hoy no estamos de acuerdo con el fin y con la intencionalidad del proyecto para lo cual se quiere facilitar el abastecimiento de los menús escolares desde la cocina

ni se puede ni se debe hacer de cualquier manera

autorización por la que solo se pueden elaborar comidas para ser consumidas en su propio centro y estoy de acuerdo en que solo hay una calle pero si modificamos la normativa para que

será para todos nuestra propia normativa y también la estatal en el caso de los comedores institucionales prohíben la extracción de alimentos y productos preparados para su consumo en comedores ajenos además no lo ha mencionado usted pero se lo voy a decir yo la cocina de la residencia

que pueda preparar con seguridad ciento ochenta menús adicionales además en ningún caso la cocina está preparada

cada vez más habituales en la población infantil en consecuencia

sin realizar previamente las adaptaciones precisas para convertir la actual cocina institucional en una cocina central adaptaciones que no son ni muy complejas

con el ayuntamiento y con la residencia donde se han estudiado posibles soluciones y

la necesidad de presentar un proyecto de adecuación de las instalaciones en el que nos constan que están trabajando badakigu

eskerrik asko presidente andrea eguerdi on guztioi señor casanova esta misma mañana

a la acción del gobierno en apoyo del sector comercial

en el eje referido al objetivo de un crecimiento sólido con más y mejor empleo se recogía el compromiso número treinta y uno que dice

de ese compromiso se recogía el apoyo al comercio local y el impulso a su competitividad como un elemento fundamental para la consolidación del empleo y la dinamización de pueblos y ciudades

ese apoyo al comercio local al comercio urbano y al comercio de proximidad programas como

el ya mencionado esta mañana hirigune dirigido a ayuntamientos y asociaciones o las ayudas para las oficinas técnicas de comercio

es limitado en cualquier caso y como ya he expuesto en alguna otra ocasión es una prioridad de este departamento preservar el modelo de comercio de proximidad tanto por razones de economía de actividad y de empleo

ello no obstante es criterio de este departamento también que en el escenario actual hay sitio para otros modelos de negocio comercial de mayor envergadura como

por ambas modalidades y aún por otras emergentes como el comercio electrónico eso sí me parece también evidente que para el ecosistema comercial vasco es necesario un equilibrio

siempre de forma equilibrada insisto no asumo sin más por tanto que una gran superficie comercial suponga automáticamente un efecto negativo para el comercio de proximidad como parece deducirse de su pregunta ahora bien las características que señala en cuanto a la ubicación y amplitud del proyecto cuarenta mil metros cuadrados de superficie ciertamente parecen romper el equilibrio al que anteriormente además de otros posibles impactos en la red viaria por concentración de flujos etcétera a este respecto traigo a colación que otros dos centros similares que existen en españa las rozas en madrid o la roca village en barcelona y estamos hablando de madrid y barcelona cuentan con diecisiete mil m y veinticuatro mil metros

parece por tanto decía que la superficie dedicada finalmente a esa actividad comercial

no a los cuarenta mil pero efectivamente me siguen pareciendo muchos aun faltando también todavía muchos elementos sobre cuál va a ser la materialización

sí señor consejero yo le pido a usted que se moje un poquitín más que no me

porque ya por ejemplo en el pleno del ayuntamiento de irun se ha votado una moción unánime con el acuerdo de todos los grupos rechazando este proyecto por el impacto que va a tener

se aprobó única y exclusivamente con los votos del partido nacionalista vasco que ostenta la mayoría absoluta y su propio partido se abstuvo precisamente entre otras cosas porque estaba en contra de este proyecto por tanto

no se ponga de perfil ante una problemática de esta naturaleza su gobierno y el gobierno anterior todos los gobiernos vienen a decir que están a favor del pequeño comercio ninguno viene a decir yo vengo a destruir el pequeño comercio y a ponerle la alfombra roja

los discursos y otra cosa es la práctica tenemos el problema de garbera que se va a ampliar

comerciales que restrinja como existía anteriormente una normativa que restringía la implantación de nuevas superficies porque todos entendemos que hay un lugar efectivamente para el pequeño para el mediano y para el grande pero algunos entendemos que los lugares

lo que vayan a captar los grandes se lo van a quitar los pequeños aquí no se va a generar

una mayor demanda porque eso está estudiado el sector del comercio es así y por tanto esto va a ser una agresión de enormes dimensiones

que estamos hablando del ayuntamiento de hondarribia gobernado por el partido nacionalista vasco con el que usted está compartiendo

o de madrid o de otros ámbitos que quedan fuera de nuestra competencia política entonces si ven que esto es un despropósito como se ve en irún como se ve en hondarribia por todos los partidos políticos

pues evidentemente se le espera a usted que tenga una actitud más contundente y que trate de poner todos los medios políticos y legales que estén en su mano para impedir que este despropósito se consume porque realmente también tenemos motivos para desconfiar de este gobierno porque ya vemos que se dicen cosas a favor del pequeño comercio y luego en la práctica

ante el pts en la pasada legislatura tuvimos la cuestión de las zonas de gran afluencia turística donde hubo un intento por parte del gobierno anterior de hacer una aplicación expansiva y donde en donostia

tenemos en bilbao también la apuesta por un modelo comercial que favorezca las grandes superficies y por tanto bueno tengo motivos para ser escéptico por tanto le pido claridad le pido una posición

a favor o en contra de este proyecto y una actuación en consecuencia con esa posición eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna retortillo jauna zurea da hitza

me pide claridad ya le he dicho creo que un criterio básico es el del equilibrio no niego la presencia

le he dicho que las informaciones que hay sobre el proyecto sobre su extensión y sobre su ubicación efectivamente parecen romper ese equilibrio pero también le he dicho y se señalaba en esa moción a la que usted aludía que las informaciones no son aún completas no conocemos exactamente cuál va a ser la dedicación

de ese macro proyecto de ese proyecto de inversión comercial que ocuparía

conozco la posición del alcalde del concejal socialista en el municipio de hondarribia en aquel debate conozco la moción que se aprobó efectivamente por unanimidad de todos los grupos en el ayuntamiento de irún y conozco también

las quejas que han mostrado algunas asociaciones de comerciantes incluso grupos ecologistas y por lo tanto vamos a seguir atentos al desarrollo de esta cuestión

ha quedado también en suspenso en uno de los elementos ha quedado en suspenso por sentencia del tribunal supremo pero también me consta que se está trabajando precisamente
en recuperar el control de ese plan eskerrik asko

buenos días a todos y buenos días también a los representantes del colectivo de médicos

la respuesta que da la consejera de trabajo y justicia a las reivindicaciones ya históricas que han planteado en más de una ocasión ante esta cámara

en su comparecencia del treinta y uno de enero de este ejercicio cuando vino a esta cámara a explicarnos cuáles iban a ser

en los dos departamentos que dirige para esta legislatura hizo un extenso discurso muy completo

todas y cada una de las necesidades que usted consideraba que tenía el departamento y dónde iba a poner usted el dedo para solucionar los problemas

y en esa larga exposición no hizo ninguna mención a uno de los mayores problemas que había habido en la legislatura pasada en el departamento de justicia que no era otro que la huelga del colectivo de los médicos forenses por eso fue precisamente por lo que todos los grupos de la oposición le preguntamos a usted qué opinión tenía sobre ese conflicto un conflicto histórico desde que fueron traspasados a la administración pública vasca los médicos forenses que prestan su servicio

el departamento de justicia en los juzgados y tribunales un conflicto enquistado

legislatura que les hizo venir a la comisión de seguridad y justicia entonces se denominaba así

unas reivindicaciones que había llevado ya a una huelga una huelga que como todas las huelgas y usted bien lo sabe que es la responsable de trabajo además de justicia

como para los cientos o miles de ciudadanos que vieron cómo sus procedimientos judiciales

por esa huelga cuando ellos nos explicaron aquí cuáles eran sus reivindicaciones que las agruparon en tres cuestiones fundamentales una la equiparación de su nivel como funcionarios para garantizar y dignificar una carrera profesional otra los tiempos de descanso que exigían

a cabo bien su trabajo después de los periodos de guardia que ellos tienen que cumplir y por otro lado

que pedían al consejero erkoreka entonces responsable del departamento para que

esas eran las tres cuestiones básicas en aquella comparecencia se vieron vituperados se podría decir

incluso por los responsables de la consejería en aquel momento en la respuesta a unas

que desde el grupo eh bildu y desde el grupo socialista se preparó una proposición no de ley que creo que usted bien conoce esa proposición no de ley la abanderaron el señor

y la señora gallastegui que también me parece que nos acompaña hoy en defensa

las soluciones que los grupos políticos que la apoyamos es decir la mayoría parlamentaria creíamos que podían poner fin a este problema ya histórico a esta reivindicación histórica del colectivo de los médicos forenses que ellos nos apuntaban que iba dirigida simplemente a la muerte del instituto vasco de medicina legal a su eliminación por completo

incorporarse a esas funciones usted no hizo ninguna mención a esta cuestión en su discurso y cuando todos los grupos le preguntamos fue como siempre muy clara y muy concisa nos dijo que se iba a sentar a negociar

en la línea que había marcado el parlamento esa fue su respuesta el treinta y uno de enero de este dos mil diecisiete

junio pasado los dos primeros puntos dice claramente que hay que dar una solución a esa petición histórica y que la solución pasa

de todos los miembros del colectivo de médicos forenses del cuerpo de médicos forenses

de la escala de la administración general de la comunidad autónoma de euskadi y su posterior valoración conforme en la monografías de cada uno de los puestos de trabajo conforme a lo establecido en el estatuto del empleado público de la comunidad

pues bien eso dijo usted qué es lo que iba a hacer dentro de ese discurso en el que apelaba continuamente al diálogo usted dijo que no era casualidad en esa comparecencia

y de justicia y que iba a armonizar ambos y usted repetía continuamente la palabra diálogo diálogo y diálogo y exhortaba a la partes en el ámbito de las relaciones laborales que son su competencia a sentarse y a negociar bien

ya unos días antes de su comparecencia habían remitido a la viceconsejera una carta pidiendo una mesa para sentarse a negociar esa carta no obtuvo respuesta esperaron un tiempo y en el mes de marzo remitieron otra carta instando de nuevo a sentarse en una mesa a negociar lógicamente

ella había defendido ella personalmente había abanderado la defensa de ese colectivo en esta misma tribuna para el que entonces era el responsable el señor erkoreka

tampoco recibieron respuesta a esa segunda carta hubo una tercera en la que lo que

solicitar a los sindicatos que se sentaran a negociar con su departamento y esa sí tuvo respuesta se convocó una reunión y la viceconsejera acudió a la reunión pero en el momento en que se hicieron las presentaciones de quién era la nueva directora y de quienes estaban presentes aparte de los representantes sindicales los miembros o representantes del colectivo de los médicos forenses se levantó

que usted en este caso como empresa como parte como responsable de los funcionarios de su departamento está pidiendo en el consejo de relaciones laborales

sindicales yo quiero centrar mi interpelación en una pregunta muy sencilla cuándo va a cumplir

dijo que iba a cumplir y va a sentarse a negociar y que iba a acordar en los términos aprobados por este parlamento y los términos aprobados por este parlamento es

proposición no de ley aprobada el trece de junio del dos mil dieciséis

y porque es que además entiendo que si esa propuesta fue defendida fue abanderada además con mucho

gallastegui entiendo que es que estará conforme con cumplirla no creo

y otra cosa se diga cuando uno se sienta en los bancos del gobierno por lo tanto yo le pregunto cuándo la va a cumplir directamente y si que no la va a cumplir me sorprendería mucho me disgustaría mucho y le preguntaría en ese caso cuándo va a cesar

por no cumplir su palabra dada a esta cámara el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete muchas gracias

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok egun on guztioi señor ruiz de arbulo antes de entrar al fondo de su interpelación permítame hacer una declaración sobre mi valoración respecto al instituto vasco de medicina legal la quiero hacer porque en los últimos días estoy escuchando

declaraciones al respecto y usted lo acaba de decir

con respecto a la pervivencia de este instituto

que todas las personas que integran el colectivo de personal al servicio de la administración de justicia independientemente de cuál sea su procedencia administrativa merecen mi consideración porque son los que hacen posible el servicio público

y lo mejoran día a día por otra parte como bien sabe el instituto vasco de medicina legal se creó dos años después de las transferencias de

el decreto aprobado en el año mil novecientos noventa y ocho y que daba luz al instituto supuso un hito

además de una referencia pionera en el resto del estado hubo problemas en los primeros momentos pero no cabe duda de que hoy contamos con un instrumento imprescindible al servicio de los juzgados y tribunales y digo imprescindible se ha constituido como órgano técnico que realiza pruebas periciales tanatológicas clínicas y de laboratorio además se ha convertido en un referente para la medicina forense en euskadi esta labor se desarrolla por personal altamente cualificado que ha seguido un dilatado proceso de expertización y profesionales que se han especializado

toda una formación complementaria retribuida por la administración vasca

inicial universitaria la conclusión de este proceso es que hoy la ciudadanía vasca cuenta con un instrumento idóneo

nuestros juzgados y tribunales puedan impartir justicia con los debidos informes y con el necesario rigor los informes de nuestro instituto vasco de medicina legal

accidentes laborales lesiones agresiones sexuales etcétera por lo tanto señor ruiz de arbulo si usted o cualquiera me preguntara hoy si podemos prescindir o no o

incluso reducir la presencia del instituto le diría rotundamente que no estoy plenamente convencida de su utilidad

al inicio que la verdadera fortaleza la veo en las personas que prestan sus servicios en el mismo voy a entrar ahora en el asunto sobre el que usted me interpela

y en especial sobre la reivindicación de las equiparaciones salariales pues en este caso quiero ser rotunda mi propósito es y dar solución satisfactoria a las reivindicaciones planteadas voy a reiterarle lo que dije en mi comparecencia que no se me ha olvidado que la tengo presente

para que en la línea marcada por este parlamento llegar a acordar con los representantes sindicales de los médicos forenses vascos unas condiciones de trabajo satisfactorias esto quiero decir sin lugar a dudas que mi referencia sigue siendo el acuerdo adoptado por una amplísima mayoría en este parlamento

y como todos sabemos se refiere a dar cauce definitivo a la deuda con el colectivo de médicos forenses y que resumidamente se concreta en equiparación salarial

y los descansos derivados de la prestación del servicio de guardia también he de precisarle que para mí todo esto está inmerso en el cuarto acuerdo regulador de condiciones laborales

por la entonces consejera señora mendia y que hoy estoy decidida a seguir llenando de contenido comprendo que tanto usted como el propio colectivo me urjan después de siete meses

pero puedo asegurarle señor ruiz de arbulo que en todo este tiempo no hemos estado parados tenga usted en cuenta que a la labor cotidiana del departamento se ha unido el trabajo de elaboración

la configuración definitiva de un departamento que nacía de la fusión de partes que antes estaban incluidas en otros dos

y que siendo consciente de la importancia que tiene para mi departamento la gestión de lo relativo a las personas propuse dividir las funciones que anteriormente recaían en una dirección la de administración de justicia en dos direcciones dando lugar a la creación de la dirección para la modernización de la oficina judicial y fiscal

que el de poder abordar de una manera más eficaz y eficiente asuntos como el que estamos tratando y conseguir una mayor especialización no obstante en los tres primeros meses de este año se fueron sucediendo diversos contactos y comunicación fluida con los representantes de la administración de justicia

el veintiocho de marzo del dos mil diecisiete en la que las partes establecieron una ruta de trabajo

posteriormente el nombramiento de la nueva directora de la administración de justicia se convocó una reunión el veintinueve de mayo a la que además de esta asistieron representantes de los sindicatos comisiones

a continuación se han sucedido desde el doce de junio reuniones bilaterales con cada uno de los sindicatos todo ello nos dará como conclusión la posibilidad de plantear debidamente en el menor plazo posible

por la que usted me interpela y otras que están sobre la mesa y que deben tener su correspondiente tratamiento hay algo que me gustaría recalcarle señoría y es que desde la comprensión del problema

de negociación no se levanten en el colectivo de trabajadores y trabajadoras falsas expectativas que puedan volver a frustrarles

sea para concluir una situación que coincido con usted se está alargando demasiado en el tiempo insisto señor

ruiz de arbulo que mis referentes para hacer la propuesta no serán otros que el cuarto acuerdo

coincidirá conmigo que con los antecedentes que existen es preciso elaborar una propuesta rigurosa que de solución a un problema con diferentes aristas algunas más delicadas que otras y para las cuales

a continuación voy a referirme a los aspectos concretos que se contienen en lo aprobado en este parlamento formación

de necesidades formativas en el que se determinen las competencias profesionales objetivo a desarrollar por el personal y se analicen las competencias actuales que son capaces de aplicar y a partir de ahí

presupuesto y validación reconozco que esta metodología científica no ha sido la utilizada en la confección de los planes formativos de los médicos forenses

se puso en contacto con el instituto vasco de administración pública para solicitarle que previera la realización de un estudio de las características que le he descrito a pesar de ello puedo decirle que desde el momento que tomamos las riendas del departamento de trabajo y justicia hemos impulsado basándonos en la propuesta de la dirección la formación continua entre el personal del instituto vasco de medicina legal

y que teniendo en cuenta la regulación estatal revisar y negociar los cambios necesarios en la instrucción de guardias

reivindicación planteada en su momento respecto a la vulneración del derecho al descanso de once horas ininterrumpidas

me lo planteo usted como especialmente relevante en su interpelación y coincido en que es el elemento troncal del asunto

tengo que decirle también que es el tema que con más precaución estamos tratando y sobre el cual no queremos volver a levantar expectativas entre el colectivo de médicos forenses y que luego puedan verse frustradas

sabe usted que el dieciocho de mayo se presentó por parte de los entonces responsables en el gobierno una propuesta que no satisfizo a los médicos forenses

y pueda ser negociada y aceptada por las dos partes acabo reiterándole mi absoluta disposición

siete meses sobre mi mesa de trabajo eskerrik asko eskerrik asko san josé andrea ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

gracias señora presidenta señora san josé el reglamento de la cámara creo que da diez minutos al interpelante

pero nadie dice que sean diez minutos obligatorios y usted ha dedicado sus diez minutos

pero no ha respondido a la pregunta que yo le he preguntado y se la voy a volver a reformular para ver si en su segunda intervención nos dice a todos una

o un no porque usted nos habla de un nivel retributivo que parece que es troncal que parece que es importante y yo le hablo de un acuerdo de esta cámara que dice claramente equiparación como mínimo nivel veintisiete bib a partir de ahí

a partir de ahí el acuerdo marco como mínimo equiparación lo va a cumplir o no lo va a cumplir la respuesta es muy sencilla si usted me dice

le vuelvo a preguntar cuándo porque ellos están aquí presentes

terminamos esta interpelación y las otras dos preguntas una sobre este mismo tema que le queda y no tiene más que reunir al colectivo que está aquí presente con la viceconsejera que está ahí cerrar las agendas y decidir cuándo se van a sentar lo podemos dejar para después del verano por qué

señora consejera es muy sencillo va a cumplir o no va a cumplir

falsas expectativas en el colectivo al que nos estamos refiriendo hoy acaso la viceconsejera levantó falsas expectativas redactando una moción que yo enmendé y que aprobó el señor arzuaga y toda la mayoría parlamentaria

alguna responsabilidad tendrán usted dijo el treinta y uno de enero que iba a cumplir en la línea marcada por el parlamento eso no es sentarse a negociar

miedo me da la imagen de diálogo o la idea de diálogo que tiene usted para las negociaciones con los trabajadores en la parte que le toca como empresa

cúmplala consigo misma señora san josé que es muy sencillo diga cuándo lo va a hacer se puede hacer es hacerlo y usted lo sabe y no es ningún quebranto económico para las arcas públicas porque señora san josé es que usted dice que

no solamente estamos hablando de un nivel retributivo y usted o lo sabe

aunque con las sorpresas que me está dando en esta mañana igual ni siquiera lo sabe

porque resulta que en el resto de administraciones que los médicos forenses pueden prestar servicio

y no se está produciendo el relevo necesario en menos de diez años más de la plantilla se habrá jubilado con ese nivel retributivo que usted quiere imponer que no negociar porque no se ha sentado a negociar todavía y han pasado ya siete meses

señora consejera lo que va a conseguir es que cualquier joven que termine los estudios de medicina que son harto complicados y quiera pensar en un puesto de trabajo

una retribución digna o más digna dentro de las administraciones públicas en concreto de nuestra administración pública vasca por lo tanto

de no responder a las preguntas de no decirnos cuándo lo va a cumplir y si va a cumplir estrictamente es que no tiene interpretaciones ese acuerdo adoptado por esta cámara si lo va a cumplir cuándo lo va a cumplir porque si no lo hace señora san josé usted va a ser responsable de certificar la defunción del instituto vasco de medicina
legal muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

señor ruiz de arbulo creo que ha quedado claro en mi primera intervención ha quedado claro que mi intención es arreglar y solucionar

y unas reivindicaciones que llevan mucho tiempo planteadas y que soy consciente de que la no satisfacción de las mismas dio origen a una situación de huelga

varios meses hoy solo le puedo decir que me voy a sentar con los médicos forenses

próximamente ya están fijadas reuniones de cara a esta negociación y desde luego se va a hacer en la mayor brevedad posible eso

no le puedo avanzar más hoy ya le he dicho que estamos trabajando en esa elaboración de una propuesta

y no queremos que se produzcan más desencuentros con ellos y por eso permítame esa discreción con respecto a cuándo se va a ofrecer

nuestra intención abordar la equiparación y la valoración de puestos

el cuarto acuerdo regulador de las condiciones creo que he dejado claro cuáles son las referencias de trabajo qué límites tenemos y la disposición del departamento a negociar a sentarnos a dialogar y a llegar a acuerdos por supuesto pero también quiero decirle que debido a la importancia que concedemos a esa labor y que también usted ha dicho que no se centra solamente en la equiparación

no se están limitando a resolver un problema de reivindicaciones por parte del personal

otras intervenciones en relación con el instituto vasco de medicina legal le voy a comentar algunas con el objetivo de detectar posibles disfunciones en materia de seguridad y salud

con la colaboración de las personas que trabajan en las dependencias del servicio de laboratorio forense de bilbao

evaluar los riesgos laborales de cada uno de los puestos y dotaciones fruto de esta actuación en abril de dos mil diecisiete se ha elaborado el documento llamado acciones correctoras que hacen referencia al servicio de laboratorio forense y al instituto vasco de medicina legal

las acciones correctoras se refieren a temas tan importantes como la seguridad la formación la información la organización del trabajo y a modo de ejemplo y dentro de la seguridad está la mejora de los mecanismos de aviso por problemas de gases como puede ser detector del nivel de oxígeno

explicativa como complemento de las mismas se realizan acciones formativas e informativas por otra parte es nuestra intención potenciar el papel del laboratorio forense

además tratando de que los médicos forenses puedan incrementar sus competencias profesionales hemos firmado con el centro de estudios jurídicos del ministerio un convenio de colaboración para que estos puedan participar en las acciones formativas presenciales relativas a la cínica psiquiátrica y estudio de adn además de continuar aprovechando

y como conclusión señor ruiz de arbulo estamos dispuestos a sentarnos a negociar con los médicos forenses

que desde luego creo que va a satisfacer sus pretensiones siempre basadas en el acuerdo que se firmó aquí con la mayoría de todo el parlamento y desde luego con el cuarto acuerdo regulador de las condiciones de trabajo eskerrik asko

espreski gorakada hori ekiditeko cuando el trabajo mata titulaba una editorial no hace mucho de un medio afín al gobierno y a decir verdad nos parece un titular apropiado para describir el contexto no vamos a ocultar

no hemos venido a hacer el agorero no vamos a ocultar la tendencia a la baja mantenida durante años con mínimos históricos en dos mil trece dos mil catorce en lo relativo accidentes laborales pero también es cierto que hay un cambio de tendencia y que en los últimos años se invierte y estamos en un aumento de accidentes laborales también mortales

estadísticas esconden bien sea por economía sumergida trabajos domésticos trabajos por cuenta propia a pesar de todas las trampas de las mutuas y a pesar

laboral cuando en seis años solamente por amianto han muerto ciento ochenta trabajadores vascos cuál es el contexto dos mil quince incremento en un ocho coma siete por ciento de accidentes laborales doscientos sesenta y siete accidentes por día

la comunidad autónoma vasca siete accidentes mortales más que en el dos mil catorce dos mil dieciséis

en un nueve coma cinco de accidentes respecto a dos mil quince doscientos ochenta y ocho accidentes por día uno cada seis minutos según osalan tres accidentes mortales más que en el dos mil quince cuarenta muertos en la cav

en la cav dos mil diecisiete datos de enero a mayo cinco meses

de los cuales catorce son mortales según osalan veintidós según

es esta la realidad y no ha habido ninguna reacción no ha habido ningún esperpento y el gobierno parece optar por seguir haciendo lo que se ha hecho

posible egiten duena qué es lo que hace posible que eso pueda ocurrir y para nosotros esa es la respuesta porque eso es precisamente lo que habrá que abordar

solamente el siete por ciento de los contratos son indefinidos de los cuales el trece por ciento no llega a fin de año de ese mismo año

de reducir la tasa de temporalidad desde lanbide se apunta también a una cierta picaresca por parte de empresarios en el que el único aliciente en la contratación indefinida la sitúan en la subvenciones que por ello obtienen la reforma laboral

que obtuvo el beneplácito tanto del psoe como del partido nacionalista vasco esa reforma que se encargó de abrir el camino a la derecha que para posteriori viniera rajoy con otra reforma

rebajas en lo relativo al despido laboral

esas reformas laborales son las que proporcionan los ingredientes necesarios para que aquí se vaya creando un caldo de cultivo necesario un magma una situación propicia para que en última instancia se den accidentes laborales y también mortales

señora consejera cero coma dos del producto

gobierno a lo que es salud laboral que el coste de la prevención

supere el coste de la no prevención también es un factor que alimenta

no hacer prevención en este país es barato muy barato

euros de sanción a empresas como arcelormittal hacen

se nos rían a la cara y eso es lo que está sucediendo

el bloqueo de la negociación colectiva una de las pocas herramientas al alcance de los trabajadores y trabajadoras para poder contrarrestar los efectos de la reforma laboral

también son factores que en última instancia

pueda haber accidentes laborales solo tres de cada diez trabajadores tienen a día de hoy convenios actualizados y en vigor la consejera en este sentido no puede limitarse a instar a sindicatos y a patronal

todos esos factores y más son fuente de precariedad estamos asistiendo a una especie de vértice superior de la pirámide

todos esos accidente laborales en una base mucho más amplia como decía por diversos factores reforma laboral es precariedad lo contrario de empleo digno y de calidad y ese es el principal problema o este ejecutivo asume su cuota de responsabilidad y sitúa la desaparición de la precariedad laboral en objetivo de primer orden o seguiremos asistiendo a muertes laborales semana tras semana queremos trasladar

de que esta batalla no se puede librar únicamente en el ámbito de la ley de prevención de riesgos laborales y osalan tal y como

múltiples factores y creemos que hay que abordarlos de manera integral por lo tanto la pregunta es qué objetivos se marca

para disminuir el número de accidentes laborales cuál es la estrategia que va a seguir este ejecutivo para disminuir el número de accidentes laborales

lo que ha expresado usted en la exposición de su interpelación está en perfecta sintonía con la preocupación y sensibilidad de mi departamento y de todo el gobierno

de atajar la siniestralidad laboral apoyando la introducción que usted ha hecho quiero manifestar dos premisas sobre los accidentes laborales una

es la expresión de un fracaso preventivo por lo tanto hay que priorizar las medidas de prevención otra que los accidentes no son producto de razones

para poder prevenirlas a modo de introducción también quiero aportarle

muestra un descenso realmente importante hemos pasado

con un índice de incidencia de ochenta y cuatro coma ochenta y ocho por mil trabajadores

personas trabajadoras de cuarenta y uno coma setenta y siete menos de la mitad se trata de un progreso descendente no lineal

y creo que es justo reconocer que además de osalan estos resultados han sido posibles gracias a una tarea en la que nos hemos implicado todos los agentes sociales patronal y sindicatos lo he dicho varias veces y lo repito hoy aquí para mí la definición de empleo de calidad no puede reducirse exclusivamente

se realizan referencias explícitas a la salud y a la seguridad laboral que conllevan el compromiso de trabajar desde el gobierno conjuntamente con los agentes sociales

acciones formativas para los delegados y delegadas de prevención en las empresas modernizando los registros y la información sobre accidentes laborales para dar

y desarrollando protocolos de detección y reconocimiento de enfermedades profesionales el empleo de calidad

esta afirmación nos obliga a seguir desarrollando un trabajo serio de participación activa en los campos de la seguridad y salud en el trabajo

y salud queda clara en la legislación nosotros como los propios empresarios no pretendemos escamotearla para nosotros no hay un número aceptable de accidentes laborales

a volver del trabajo a su casa en las mismas condiciones en las que partieron y además que al finalizar su vida laboral y acceder a su jubilación

y los medios y los productos con los que han trabajado son bien comprobables los avances realizados por las empresas de nuestra comunidad en materia de seguridad y salud en el trabajo y la progresiva concienciación de los agentes y de la sociedad respecto a esa prevención pero no se puede ignorar que todavía queda mucho camino por recorrer

ocasionalmente y las alertas suscitadas por algún brote de enfermedad relacionada con su exposición laboral nos lo recuerdan día a día la prevención de los riesgos laborales para mantener e incluso promover la salud de las personas trabajadoras debe estar basada en evitar al máximo todos los riesgos que supongan la posibilidad de sufrir accidentes y la

además de vigilar estrechamente las desviaciones de salud y promover una cultura de prevención de riesgos laborales en definitiva el accidente y la enfermedad

sea del tamaño que sean los ciudadanos con sus impuestos y el gobierno con su propuesta y tras la aprobación presupuestaria dedican como compromiso a la salud y seguridad catorce millónes de euros a través

quiero recordar que en este sentido no ha habido ningún recorte en esta materia pero quiero advertirle que el gasto en prevención es inversión y sé que comparte conmigo esta afirmación la formación de los delegados y delegadas de prevención forma parte de un capítulo que consideramos básico en nuestro trabajo de prevención

han sido formados al finalizar dos mil dieciséis y es una cifra que responde a este compromiso que le estoy diciendo

programado formación para al menos un millar de delegados y delegadas de prevención

es fruto de una amplia participación en su elaboración esa estrategia es un referente para configurar los planes de gestión que anualmente establecemos con el máximo consenso señoría precisamente en estos momentos estamos acabando de consensuar con los agentes sociales el plan de gestión que osalan recientemente ha elaborado

martes veintisiete de junio no tengo tiempo para detallarle pormenorizadamente todo el contenido pero puedo adelantarle que dicho plan contiene cuatro ejes de trabajo

de los ejes y áreas de actuación eje uno cultura de prevención de riesgos laborales con dos áreas de actuación concienciación y sensibilización eje dos generación y difusión de conocimientos sobre seguridad y salud laborales con cuatro áreas de actuación información investigación formación y difusión del conocimiento eje tres gestión de la prevención de riesgos laborales actuando en tres áreas

mejora de condiciones de trabajo e integración de prevención de riesgos laborales en la gestión y el cuarto

interinstitucional quiero destacar también nuestro compromiso con la investigación a fondo de los accidentes laborales investigar es buscar las causas por las que se ha producido y encontrarlas asegurando así la disposición de medidas para que esto no vuelva a suceder

y las que vamos a implementar en un futuro próximo eskerrik asko eskerrik asko san josé andrea urruzuno jauna zurea da hitza

eta beste faktore batzuengan eragitea mira señora consejera te voy a enseñar un titular de prensa que no tiene nada que ver es de esta semana con el tema que nos ocupa y dice

acogida de refugiados volviendo al tema que nos ocupa traducido al tema que nos ocupa sería el gobierno vasco plantea vincular los fondos vascos a empleo de calidad es decir no hay fondos para quien no invierte en empleo de calidad no hay fondos para quien fomente la precariedad y no porque creamos que no deba haber fondos

condiciones una pregunta al respecto variante sur ferroviaria cuáles van a ser las condiciones después de haber asistido a semejante

no sé cómo llamarlo a semejante despropósito en musikene en las obras de san mamés

cuáles van a ser las condiciones en la variante sur ferroviaria por poner un solo ejemplo prekarietatea estrukturala da zuek kalitatezko enpleguaz

lan harremanetarako euskal lan esparrua marco vasco de relaciones laborales creemos desde eh bildu que ese marco

todas las herramientas necesarias para poder abordar

también el tema de los accidentes laborales desde una perspectiva integral también debe de ser a nuestro entender un tema para la ponencia de autogobierno es decir tal y como nos

los dos sindicatos mayoritarios no hay autogobierno sin marco vasco de relaciones

desaguisado si el gobierno pretende tomar esto como

vuelvo a manifestarle mi preocupación y mi ocupación por atajar un problema que merece la máxima prioridad política y social

de los trabajadores se alza como valor fundamental de primera magnitud que no puede ceder

en este sentido afirmo que independientemente de las condiciones laborales de la contratación lo que va a reducir la siniestralidad laboral es que en la empresa existe un modelo preventivo real y efectivo que garantice la seguridad y salud laborales del personal y es bajo esta premisa en la que también sumamos

asesoramiento técnico empresarios y personal trabajador para aumentar las condiciones de seguridad en los centros de trabajo vigilancia y control en las empresas

correctoras que prevé el ordenamiento para los supuestos de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales requerimientos de subsanación propuestas de sanción paralización de actividades peligrosas etcétera la realización de campañas de vigilancia y control en materia de prevención de riesgos laborales supone una apuesta decidida

las condiciones de seguridad que garanticen esa seguridad y esa salud en los trabajadores para ello se ha diseñado una intensa planificación de actuaciones

por la incidencia que pudiera tener en materia preventiva no las voy a detallar todas tenga la seguridad que corresponden a un análisis profundo sectorial también hemos planificado para la inspección de trabajo una campaña específica que consiste en garantizar entornos de trabajos seguros

a las causas que permiten su celebración el control de las horas extraordinarias la campaña específica de control de la cesión de trabajadores de empresas de servicios y este

agentes sociales y trabajadores ha de conseguir avanzar decididamente en los objetivos que hemos señalado de disminución de la siniestralidad me he negado y me negaré a discutir un número mayor o menor de accidentes laborales mortales la precariedad laboral no es buena compañera de la baja siniestralidad

y es por ello que también debemos seguir combatiendo la precariedad la formación la inversión en seguridad el compromiso patronal al que corresponde velar por la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras los esfuerzos de los sindicatos deben tener una línea ascendente y desde luego en osalan comprobamos la actividad de los que tienen

es seguir trabajando cada día mejor para evitar la siniestralidad y mejorar la investigación de los accidentes mortales para que no vuelvan a suceder con respecto a los foros en los que

le diré que cualquier foro al que se lleve este asunto será bueno porque estaremos implicando a todos los sectores y a todos los agentes

con respecto a si tenemos claro cuáles son las competencias de trabajo cuáles son las competencias

coordinadas en un tema que es fundamental

esa seguridad y salud en el trabajo y desde luego garantizar esa calidad en el empleo eskerrik asko

traer de nuevo a esta cámara porque pensaba que tenía que estar ya resuelto

esperanzador es inspirador ver a un colectivo que mantiene la lucha que mantiene el pulso por una causa que resulta ser razonable legítima y justa

es económicamente más que viable porque tiene implicaciones presupuestarias ridículas es legítimo ante la gran responsabilidad que tienen en sus manos

por ser juristas y por participar en la administración de la justicia y es justa porque estos médicos solamente están solicitando ser

sentirse con pleno derecho dentro de la administración pública vasca es decir

he estado escuchando la interpelación que ha planteado el señor ruiz de arbulo y usted señora consejera nos decía que les llevará una propuesta para satisfacer sus pretensiones y yo creo que solo cabe una propuesta para satisfacer sus pretensiones

pnl del trece de junio de dos mil dieciséis ahora escasamente hace un año y que tiene una concreción

una respuesta con una concreción rotunda esa pnl dice vamos a reconocer

y yo lo que le solicito lo que le exijo con una concreción rotunda es que diga vamos a reconocer

y a partir de ahí empezaremos a proveer sí o no porque no hay más variables eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

que acaba de hacerme el señor ruiz de arbulo del grupo popular por lo tanto disculpará

ya los ha escuchado en mi anterior intervención quiero manifestarle que mi actitud ante los médicos forenses como lo es hacia todo el personal y que depende de las áreas que dirijo

para solucionar los problemas pendientes o los que puedan surgir en el futuro dicho esto le reitero que desde que tomé las riendas del departamento de trabajo y justicia las reivindicaciones

en la justificación a su pregunta hace usted un resumen acertado de cuáles son los asuntos a resolver hablaba de presentación de un plan de formación hablaba del respeto de las horas de descanso tras las guardias y sueldos dignos

a los médicos forenses coincido con ellos en la necesidad de elaborar un plan de formación que les permita ampliar sus competencias profesionales y para ello qué mejor

con métodos acordes a una gestión avanzada de recursos humanos ayudará a solucionar este problema

quiero decirle que como prueba del asunto que nos preocupa y ocupa durante el año dos mil dieciséis se invirtieron por parte del departamento seis mil ochocientos setenta y uno euros

más del doble que en doce sobre los descansos tras las guardias sabe usted señor

no se dan reclamaciones por el parte del colectivo y las de disponibilidad

presencial salvo en momentos puntuales en este caso ha habido discrepancias sobre la aplicación de la normativa que exige el descanso de once horas desde la actuación durante la guardia puede decirle que

posible al trabajador y trabajadora y prueba de que nos estamos acercando a lo que plantean los médicos es que no ha habido reclamaciones en los últimos meses pero hay más señorías los propios trabajadores reconocieron en su comparecencia pública de esta misma semana que habían

conmigo que no es por casualidad y que algo tendrá que ver la actitud proactiva que le mencionaba antes

equiparación salarial una reivindicación que como he dicho y he repetido se aplicó al resto de cuerpos de la administración de justicia con la firma del cuarto acuerdo y quedó pendiente de aplicar los médicos

lo que le he dicho al señor arbulo que estamos trabajando en esa propuesta que ha de ser rigurosa y por supuesto que será satisfactoria y en el momento que la tengamos elaborada

algo más de un minuto creo entonces espero que en el segundo turno me dé la concreción a la pregunta que yo le estoy lanzando y es

de veintisiete iib para a partir de ahí proveer o es otra propuesta

la que les va a cursar usted dice están en mi consideración

están reclamando lo que están reclamando es que esté en su actuación

interpelación anterior nos ha hablado de que va a hacer una valoración de puestos de trabajo bien pero en todo caso va a ser después

de que no se ha respondido con suficiente nitidez con suficiente claridad también uriarte dijo que se haría una valoración de puestos de trabajo

el famoso si no lo digo reviento entonces hoy me voy con la preocupación si usted no me aclara de si no interpreta esta

usted no les va a generar falsas expectativas porque es suficientemente claro y da un mandato tan expreso y tan rotundo como decir el departamento de justicia reconocerá para todos los funcionarios y funcionarias del cuerpo de médicos forenses

general de la comunidad autónoma vasca no hay margen no se puede interpretar por lo tanto le reitero concreción

yo creo que he sido clara al respecto mi firme voluntad de resolver este problema

el acuerdo de este parlamento ya lo he dicho y el acuerdo de condiciones de trabajo del personal al servicio de la administración de justicia yo creo que he sido bastante clara al respecto

y desde luego nos vamos a sentar a negociar esa es mi respuesta eskerrik asko san josé andrea gai zerrenda agortu dugunez osoko bilkurari